legebiltzarkideok egun on guztioi los socialistas vascos apoyamos en su día la querella abierta ante un juzgado de buenos aires por delitos de lesa humanidad

porque pensamos que son delitos que no prescriben y sobre los cuales

el veinte de junio de dos mil trece este parlamento aprobó por mayoría apoyar la querella cuatro mil quinientos noventa y uno barra diez instruida por la jueza

titular del juzgado número uno de buenos aires y posteriormente en diciembre del mismo año una delegación de la comisión de derechos humanos de este parlamento estuvimos presentes

consecuentemente con ello hoy vamos a instar al gobierno español la normativa internacional sobre derechos humanos y abandone la actitud dilatoria y obstruccionista que está teniendo ante los requerimientos efectuados por el juzgado argentino

a posibles responsables de crímenes cometidos durante el franquismo la vía penal para el esclarecimiento de los delitos perpetrados por el franquismo y la condena en su caso de los responsables

en el estado español apoyamos esa vía porque creemos que se debe seguir intentando

pero es una forma de cerrar un círculo durante tanto tiempo abierto

pero aparte de tomar posición sobre este asunto hoy quiero reivindicar lo que desde mi punto de vista ha permitido que nos encontremos ante esta posibilidad de justicia para las víctimas quiero reivindicar dos actos legislativos hay más pero estos me parecen los más los que han supuesto avances en esta línea en el desarrollo de la memoria histórica el primer hecho legislativo

por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura este fue uno de los muchos impuestos en el terreno de las libertades

se dirá que esta ley llegó tarde y para algunos es posible que se quede corta pero nadie puede negar que supuso un hito

hasta la aprobación de esta ley se habían impulsado iniciativas por diferentes comunidades autónomas en lo que se refiere a actividades de memoria histórica

la que amplía los supuestos de reconocimiento y concreta medidas en diferentes campos de investigación y recuperación de la memoria desde que se aprobó esta ley y durante los años en el que el presidente del gobierno fue rodríguez zapatero

y para realizar trabajos de localización más de doscientos fosas fueron exhumadas y cientos de familias pudieron recuperar

hoy ante la actitud regresiva del gobierno del pp esta labor está sostenida por la implicación de algunas comunidades autónomas y por la iniciativa privada en ese mismo periodo de tiempo más de cien mil personas descendientes de españoles exiliados han podido recuperar la nacionalidad española por fin

a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos como los combatientes guerrilleros o los integrantes de las brigadas internacionales

a la nacionalidad española sin renunciar a la suya en una medida quizás más moral que efectiva por la edad que tenían ya

de esta forma se pudieron unir en la reparación a los miles de milicianos que junto con el ejército regular de la república lucharon para preservar la democracia en españa podríamos hablar también de las disposiciones contenidas en la ley para la supresión de símbolos y monumentos conmemorativos del franquismo

de los tribunales de la dictadura el contenido de la ley denominada de memoria histórica abarca muchos más aspectos como el reconocimiento personal rehabilitador y reparador

a recibir por las víctimas creo que es un buen ejemplo de que si se tiene voluntad política se puede avanzar hacia la verdad

de crímenes durante el franquismo es en buena parte debido a la actitud pionera de un gobierno socialista

quiero referir es el decreto ciento siete barra dos mil doce de doce de junio

como respuesta a una iniciativa de este parlamento y que concretó el departamento de justicia y administración pública

con aquel decreto se pusieron en marcha medidas destinadas a reconocer y a reparar el sufrimiento de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de vulneración de derechos humanos producidos

en el contexto de violencia de motivación política en estos años han sido casi doscientos las personas que han podido verse reconocidas y reparadas con sufrimientos injustos ocurridos en nuestra comunidad autónoma

pudimos asistir al primer reconocimiento institucional y público a las víctimas del período franquista acotados a los años que marcaba el decreto es cierto pero pienso que no por ello menos significativo tanto la querella objeto de la iniciativa que tenemos en el orden del día

como el decreto del gobierno vasco dirigido a reparar vulneraciones de derechos humanos como

como cualquier otra que vaya en favor de la reparación y de búsqueda de la justicia deben ser constitutivas de un relato veraz nuestra obligación

que permita a las generaciones jóvenes conocer su historia que no olviden porque el olvido de la historia se condena con su repetición eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna

esan ditu el tiempo pasa la impunidad permanece txostenean la impunidad ha dejado a las víctimas de crímenes de derecho internacional en una situación

ricardo algar felix criado pascual honrado jesús martínez benjamín solsona atilano del valle abelardo garcía utrera molina antonio carro higinio de la fuente

kriminal babestuak parto de una constatación

protegen y dan cobijo a los criminales del franquismo primero porque deniegan la investigación en tribunales ordinarios

en base a la justicia universal españa ha roto ese principio internacional

es decir o juzgas o dejas juzgar o juzgas o estraditas

tercero la fiscalía general del estado ha llegado incluso a mentir al tribunal argentino diciendo que estos hechos están siendo investigados mentira cuarto

para así mejor proteger a esos criminales quinto

como tapón para que no se investiguen crímenes de lesa la onu ha solicitado en repetidas ocasiones a españa la derogación de esa ley de amnistía lo hizo el comité de derechos humanos en el dos mil ocho en la sesión de exámenes periódicos al reino de españa lo hizo en el dos mil doce

que señaló que españa estaba obligada a derogar dicha ley y a investigar las graves violaciones contra los derechos humanos del pasado

unidas para la promoción de la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición

haciendo caso omiso de toda esta exigencia externa

se opone a los requerimientos de organismos humanitarios a los requerimientos de la justicia universal

aislándose voluntariamente de la comunidad internacional sigue haciendo una interpretación sesgada de soberanía la soberanía

la soberanía para hacer lo que quiera en materia de derechos humanos la soberanía para dar cobijo a criminales de gravísimos delitos contra la humanidad

es una obligación jurídica para los poderes del estado

a jueces y magistrados aplicación que se está viendo vulnerada de forma reiterada hasta por el propio tribunal supremo que en su sentencia ciento once barra dos mil doce de veintisiete febrero

no deben investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo y lo hace amparándose en la prescripción de los delitos en el fallecimiento de las personas presuntamente culpables

que los delitos de lesa humanidad como por ejemplo las desapariciones forzadas son imprescriptibles y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto suscrito por el estado español

obligatoria en el propio estado que las desapariciones forzadas deben ser investigadas hasta conocer la suerte de la víctima el estado

no puede ni debe invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado máxime

ha firmado los citados tratados y recoge expresamente en su carta magna su cumplimiento en el caso de españa la constitución española lo hacen los artículos diez y noventa y seis

dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración universal de los derechos humanos

ratificados por españa el comportamiento de los poderes públicos españoles en definitiva no tiene justificación ni jurídica ni ética ni desde el punto de vista de la convivencia democrática debiera haber sido la justicia española quien investigase los hechos

a las víctimas de la verdad justicia y reparación pero si no es así si la justicia española no quiere o no puede hacerlo

porqué poner palos en la rueda de la justicia y la reparación a estas víctimas por eso la proposición de ley que presentamos los grupos socialistas vascos euskal herria bildu y nacionalistas vascos

esta actitud obstruccionista del gobierno español para atender los varios requerimientos hechos hasta la fecha

a posibles responsables de crímenes cometidos durante la dictadura franquista

a respetar y a asumir la normativa internacional sobre derechos humanos así como las recomendaciones del comité de derechos humanos de naciones unidas es en casos como estos

en los que se entiende el interés del gobierno español del partido popular por acabar en españa con la justicia universal uno de los mayores errores de la legislatura pasada en

y la convivencia sin memoria que todas las víctimas tienen derecho a la verdad la justicia y la reparación

lehendakari consejeros señorías buenos días a todos esta es una cuestión de la que ya hemos hablado en esta cámara sobre

distintas iniciativas de siete de junio de dos mil trece presentada por estos mismos tres grupos del veintiocho de mayo de dos mil quince

y fueron debates dónde quedaron claras las posturas y las posiciones este es un paso más que dan ustedes pero la respuesta en nuestro caso debe de seguir siendo la misma la ley de amnistía de mil novecientos setenta y siete

ni un perdón fue una solución democrática en el contexto de una transición política que para nosotros es una referencia de convivencia y sobre todo es una referencia

de no repetición una ley de amnistía alguien hablaba de hecha medida de de amnistía hecha a medida de diferentes opciones y partidos políticos hecha medida

del partido comunista del partido socialista obrero español del partido nacionalista vasco etcétera etcétera hecha medida

y decidida en cortes por esos partidos la aprobaron efectivamente nosotros queremos seguir reivindicando los acuerdos de la transición española entre los que figura como asumida por las fuerzas políticas democráticas como esencial

numerosas resoluciones judiciales que hoy mismo lo sigue haciendo que es una ley en vigor integrada en el ordenamiento jurídico español

que cualquier responsable político debe reconocer y asumir y cualquier responsable judicial y si es un miembro del gobierno o si es el gobierno de españa especialmente es una ley que fundamenta sus actuaciones

como los tribunales sus actuaciones en el derecho y en las leyes mi grupo está totalmente de acuerdo con cuestiones relevantes en cualquier caso como el

el resarcimiento a las víctimas del franquismo ya lo hemos dicho en otros debates parlamentarios ya lo hemos pronunciado

en relación con el estudio la memoria histórica la verdad de lo ocurrido y su conocimiento y por ello siempre hemos valorado hemos considerado

de la universidad de las sociedades científicas que trabajan por esa memoria y por esa verdad el señor

y yo creo que son de valorar y son de seguir impulsándolos y

lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo décimos en la enmienda a la totalidad que hemos presentado a la iniciativa que debatimos lógicamente condenamos todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en este país y por supuesto entre ellas están las de la dictadura y por ello nos solidarizamos con todas las víctimas y con tantas víctimas inocentes del franquismo de la dictadura y de la propia guerra civil defendemos y debemos de respetar y defender el estado de derecho

alcanzados en nuestra historia democrática eso para nosotros es un principio de actuación

desde luego pues entenderán además ustedes que no podemos apoyar

por este parlamento por cumplir la ley y por pedir que se cumplan las resoluciones de los tribunales por eso

esta iniciativa nosotros no vamos a denunciar desde luego al gobierno de españa por entendiendo como entendemos que aplica el ordenamiento jurídico y

judiciales en relación con las cuestiones que ustedes tratan pedir también al gobierno lo que piden en el tercer punto nosotros entendemos que el gobierno ya lo hace

permanentemente en materia de derechos humanos entendemos que lo han hecho todos los gobiernos en españa y que lo hace también escrupulosamente actualmente y es que es su voluntad

efectivamente no se es infalible y puede haber habido problemas o puede haber habido defectos pero en cualquier caso el propósito del gobierno de españa como el de gobiernos autonómicos efectivamente pues lo conocemos y lo entendemos

eso ha hecho referencia de ello y nosotros estamos convencidos de lo mismo ya hablamos recientemente en esta cámara de los informes de especial y las cuestiones jurídicas y políticas que planteó y sobre las que el gobierno

no las eludió el gobierno de españa no las eludió sino que las contestó y las

en las actuaciones de la justicia española de las leyes de los tribunales del espíritu de la transición y en ese sentido hubo referencias y contestaciones como todo se debate y se aplica además he de decir que una de las cuestiones en relación con los informes relatores especiales

y legales en la medida de las posibilidades eso también es un compromiso eso también está ahí y

es un tema que ya es conocido y del que ya

en definitiva lógicamente no podemos votar a favor de esta enmienda esta iniciativa que trata de denunciar al gobierno de españa

apoyar y en ese sentido pues nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad cuyo primer punto pues sí es cierto que es similar al suyo

su reconocimiento a todas las víctimas generadas por la guerra civil española y la dictadura franquista nosotros hablamos en el segundo punto de que el parlamento vasco manifieste la importancia histórica de la ley de amnistía de mil novecientos setenta y siete y respeta las decisiones de los tribunales españoles

de primero de derecho tercero el parlamento vasco insta al gobierno de españa a que se mantenga en el cumplimiento de la normativa internacional sobre derechos humanos y a que tenga en cuenta las

y como cuarto punto hablamos de que el parlamento vasco

sociedades científicas que han trabajado en el ámbito del referido contexto histórico

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor consejero señor

repasemos aunque sea sucintamente los hechos históricos y hagamos una breve cronología de lo que ha ocurrido durante las últimas décadas en españa

fascista la dictadura los crímenes y la ausencia de libertades la lucha por las libertades de una parte de la sociedad española la transición pero también la ley de amnistía la ley de memoria histórica y en los últimos tiempos la pretensión de algunos de traer rencores por simples intereses partidistas el golpe de estado de julio de mil novecientos treinta y seis fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la

y cuyo fracaso parcial condujo a la guerra civil española y derrotada la república el establecimiento de la dictadura de franco que se mantuvo en el poder

por tanto se produjo un alzamiento fascista y antidemocrático contra un gobierno legítimo que ha sido reiteradamente condenado por esta cámara

sabemos la cruenta represión la vulneración de derechos básicos y de las libertades ciudadanas la dictadura los

que tienen toda nuestra consideración solidaridad y apoyo y también la lucha por las libertades democráticas y el compromiso contra la dictadura y en favor de la democracia

la ley de amnistía un importante sector político jurídico y de opinión pública donde se sitúa upyd sigue considerándola como un logro de la oposición democrática al franquismo

por los españoles desde mil novecientos treinta y seis habría que saber a día de hoy qué es exactamente lo que el partido socialista obrero español piensa de la ley de

introducir reformas legales o incluso la propia derogación de la ley de amnistía si esto efectivamente es así si el partido socialista obrero español piensa exactamente esto que hay que derogar la ley de amnistía yo creo que el escenario más

es el congreso de los diputados si el partido socialista piensa esto creo que debería hablar o entablar diálogo con los principales partidos políticos españoles para proponérselo y explicárselo es un asunto lo suficientemente relevante como para que no se debata en el congreso de los diputados por tanto nosotros lo que pedimos al partido socialista es que aclare su posición en relación a esta cuestión

en un parlamento autonómico y en fin y bastante lamentable por otro lado hacerlo de la mano de eh bildu esto creo que exige un debate mucho más a fondo

su posición en relación a esta cuestión lo cierto es que ya en julio de dos mil once el bloque nacionalista galego presentó en el congreso de los diputados una proposición para derogar

el resultado fue de ocho votos a favor de la derogación trescientos veinte en contra y ocho abstenciones el partido socialista obrero español resaltó que la ley fue la forma de superar las guerras civiles y que el olvido era recíproco para ambos bandos

el historiador santos juliá recientemente escribía que la ley de amnistía de octubre de mil novecientos setenta y siete quiso simbolizar el comienzo de una nueva era de concordia que algunos parece ser que quieren romper se trajo el pasado al presente pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia a la pregunta de si fue la ley producto de un amnesia o causa de un olvido responde este historiador que en absoluto impuso

los objetivos de aquella ley de amnistía sacar de la cárcel a todos los presos de eta y a cambio extender la amnistía a autoridades funcionarios y policías

amnistiar el pasado de todos para construir un país nuevo en el que todos podamos vivir

antes de ella en ella y después de ella hasta nuestros días en palabras de julio jáuregui representante del partido nacionalista vasco

el catorce de octubre de mil novecientos setenta y siete decía cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros sino

la amnistía decía es una política nacional y democrática la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas queremos abrir la vía

queremos cerrar una etapa y abrir otra

tenemos está vigente la ley de memoria histórica que nosotros reivindicamos y apoyamos una ley que prevé medidas para que las administraciones públicas faciliten en el marco de sus competencias a quien lo solicite tareas de localización e identificación una ley que amplía las cuantías de las indemnizaciones percibidas que declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas que establece medidas para eliminar símbolos del franquismo o que amplía

de que la recuperen una ley que sirve para hacer justicia para compensar y para investigar y que reconoce el derecho a la memoria personal y familiar

y pedir además que se siga desarrollando y que tenga un mayor alcance recorrido impacto que el que ha tenido en los últimos años también cabe decir que a lo largo de los últimas décadas han sido decenas los decretos que se han aprobado para

de los represaliados desde los militares que lucharon junto a la república hasta los llamados niños de la guerra pasando por los que perdieron su condición de funcionarios públicos y también

actuaciones ciertamente interesantes de justicia que nosotros apoyamos lo que se nos plantea ahora entendemos nosotros choca con la ley de amnistía eh bildu partido nacionalista vasco y el partido socialista nos propone que apoyemos la querella

contra el franquismo no dudo de las buenas intenciones de algunos de los firmantes y que quieran reclamar justicia

los responsables de semejantes crímenes paguen por ello o al menos sean señalados no dudo de algunos de los firmantes pero entendemos nosotros que aquí hay dudas jurídicas que son más que evidentes y que en concreto esta propuesta choca claramente con la ley de amnistía por otro lado como

hace apenas dos meses reconocía en el parlamento de asturias cuando una iniciativa semejante se debatió en ese lugar el portavoz socialista fernando lastra explicaba que si su grupo apoyaba la proposición

y por respeto pero insistió en que lo que el país necesita es concordia y pasar página este diputado asturiano señalaba además las dificultades que cuenta la proposición por razones jurídicas debido a la ley de amnistía

el diputado socialista de asturias decía expresamente esto en un debate reciente en concreto del pasado día diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis decía además este diputado socialista hay buenos diputados socialistas

tengo clara constancia de ello este asunto no puede ser utilizado como arma arrojadiza de unos demócratas a otros todo esto se decía

y esto es lo que yo planteo en este debate ya digo algunos argumentos podemos compartirlos hay que hacer justicia resarcir a las víctimas señalar a los culpables de semejantes crímenes pero

es aclarar cuál es su posición en relación a la ley de amnistía y de paso si comparte las palabras del diputado asturiano desde luego nosotros condenamos

durante las cuales el régimen se mantuvo y ejerció su tiranía apoyamos a las víctimas su reconocimiento y la verdad histórica de esto no hay ningún tipo

de amnistía más allá de que incluya como digo reivindicaciones que nosotros podemos compartir

estamos más cerca de la enmienda planteada por el grupo popular nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

es que nosotros cuando hemos firmado esta iniciativa en ningún caso queremos utilizarla como arma arrojadiza contra ningún demócrata eso le quede claro desde el minuto uno nosotros hemos firmado esta iniciativa primero y le he dicho en mi primera intervención porque estuvimos de acuerdo la querella que se había abierto en el juzgado número uno de buenos aires y precisamente usted y aludiendo a ese diputado a ese compañero de asturias decía que hay dudas jurídicas nosotros lo que creemos es que cuando una jueza de un juzgado de buenos aires abre esta querella asume esta querella es porque está haciendo que prevalezca la jurisdicción internacional

sobre la legislación particular española y nosotros nos basamos en eso y por eso nuestra actitud ante la ley de amnistía no se basa en lo que tengamos que hacer sobre ella sino que pensamos que prevalece la jurisdicción internacional y pensamos que ante un juzgado

y eso es lo que estamos diciendo hoy aquí no estamos discutiendo y si usted se lee

que vamos a aprobar en ningún caso se habla de la ley de amnistía se habla de la prevalencia de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos y ya se han explicado antes

de naciones unidas desde el consejo de derechos humanos de naciones unidas que insta al gobierno español a que se respete

simple y llanamente eso por qué porque efectivamente queremos que también aparte de la reparación y yo me he referido largamente en mi primera intervención a la ley de memoria histórica

y para señalar como usted decía a los culpables de aquellos delitos debe prevalecer y como pensamos insisto que es la jurisdicción internacional

y no nos hemos metido ni en la proposición ni en el debate en lo que es la

y con respecto a la ley de memoria histórica el señor barrio y usted mismo

han hecho han enaltecido de alguna manera

pero para que una ley como esta se desarrolle hay que ponerle fondos hay que ponerle partidas presupuestarias para que se desarrolle mire cuando ha habido en un país

un país en el que están catalogadas dos mil y pico fosas de las cuales en el periodo antes me he referido se sumaron doscientos y en el periodo total son unas trescientos noventa todavía quedan

en los últimos cuatro años del gobierno del pp porque no se ha puesto un solo euro en los presupuestos generales a las asociaciones y las iniciativas tanto públicas como privadas para que se siga con esa labor eso es lo que nosotros queremos hacer las dos vías la vía penal en función o sosteniéndonos en el derecho internacional y la vía administrativa que

para que esa ley que usted tanto tan buena impresión tiene de ella hay que poner euros en las partidas presupuestarias muchas gracias

baina hemen ikusiko dugun naziak edo faxistak babestu egingo direla me parece profundamente contradictoria la enmienda que trae el partido popular porque no se puede manifestar a la vez la importancia histórica de la ley de amnistía

que se remuevan los obstáculos que esta está imponiendo para que se pueda llevar a la práctica la justicia el reconocimiento y la reparación

de mil novecientos setenta y siete una ley preconstitucional la última ley de cierre del franquismo y no voy a entrar a hablar de cuáles son las circunstancias de entonces sino hablo

que ha llevado la aplicación de esa ley una ley que cierto sacó de prisión a luchadores antifascistas a luchadores antifranquistas pero no antes de que hubiesen sido perseguidos de que hubiesen sido torturados detenidos procesados sin garantías castigados en algunos casos incluso

al mismo tiempo esta ley se está aplicando sin persecución sin detención sin proceso sin investigación sin enjuiciamiento de esos criminales fascistas

nos están solicitando que trabajemos en dos direcciones una primera para mejor reconocerles y es por eso que han comparecido también en la comisión de derechos humanos para expresar sus expectativas y aspiraciones en torno a esa ley de víctimas de vulneraciones de derechos humanos que estamos tramitando

los perpetradores sean llevados ante la justicia y es precisamente a eso a lo que la posición del pp parece que acompañado por upyd quieren cerrar la puerta ustedes invocan la ley de amnistía y parece que nos quiere meter una interpretación

legalista y no me lo creo porque siempre pienso que cada vez que se invoca una ley antes que esa ley hay una causa que es la que se pretende defender por medio de esa ley no se invoca una ley si no hay una motivación o una posición previa a defender a través de esa ley

porque creo que lo que ustedes hacen es utilizar esa ley para defender a criminales del franquismo porque comparten con ellos

ideológico porque los consideran de un mismo tronco

misma sensibilidad política ustedes se enfadaron mucho en una anterior situación en la que les acuse de falangistas o corrijo no se enfadaron tanto pero fue señor maneiro el que les

para que hicieran una protesta airada hoy vienen a defender a aquellos perpetradores de delitos de lesa humanidad hoy vienen a dar refugio

pero hoy les confronto a una circunstancia a quedarse solos como cómplices de esos criminales franquistas o a solicitar junto con esta cámara que se pongan a disposición de la justicia suya es la decisión

en mi primera intervención dos aspectos que son fundamentales en este debate por una parte la

delitos y por otra la imposibilidad de alegar legislación interna e para incumplir lo establecido en pactos internacionales firmados por

por lo tanto aun cuando la referencia a la ley de amnistía fuese hecha con buena fe pues no tendría sentido pero yo creo que la interpretación

es una es una perversión jurídica y una perversión moral

el portavoz del grupo nacionalista vasco en el congreso en un debate parecido a este sobre la querella

entonces impulsada por los sectores democráticos en el estado español que tuvo que vencer no pocas resistencias que venía que intentaba reparar en una parte en una parte las injusticias y las graves violaciones de derechos hechos desde la legalidad

que también era legalidad no era legitimidad pero era una legalidad y en el setenta y siete los legisladores y aquí se hacía referencia a varias discursos o a palabras pronunciadas

hicieron como todos en cada momento hicieron lo que pudieron en el año setenta y siete en una sociedad que salía

por un ejército que había soportado había impulsado y había soportado esa dictadura la

que se ha hecho se ha retorcido vergonzosamente hasta vulnerar el espíritu que pretendía el legislador pretendía

a aquellas personas que tuvieron que fueron cuyos derechos fueron violados

y lo hace desgraciadamente con el objetivo contrario ahora con el de proteger a aquellas personas que tuvieron responsabilidades en la dictadura franquista y

los delitos que a cuyas víctimas venía a reparar la ley de amnistía la ley de amnistía del setenta y siete no quiso ser la ley de punto final

del ochenta y siete que por cierto fueron luego corregidas vueltas a corregir

y al final llevadas a su justa situación

acudir todas las sociedades que se han visto sacudidas por conflictos de este tipo a la de la verdad a través

no pretendía ser una ley de punto final pretendía restablecer los derechos

en aquel momento por la dictadura franquista no proteger los derechos de los franquistas que les habían metido presos

echar un manto sobre lo sucedido puede servir para pretendidamente aligerar un duelo pero solo sirve para un momento es un espejismo

los duelos que no se han hecho bien siempre acaban saliendo y eso es algo que en de lo que en este parlamento estamos persuadidos y hemos firmado

pronunciamientos en ese sentido en relación con nuestro pasado reciente con la actividad terrorista de eta con las víctimas etcétera esos mismos principios ese mismo espíritu debe servir para cerrar

sufrido y reparar a todas las víctimas porque haya pasado el tiempo o no hay víctimas que siguen reclamando sus derechos

que siguen siendo familiares de desaparecidos forzados y que tienen derecho protegido internacionalmente

a los principios de verdad justicia y reparación nada más y muchas gracias eskerrik asko iturrate jauna

gracias presidenta sí señor iturrate y estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con el

con el conocimiento de la verdad con la historia con profundizar científicamente la misma y conocerlo cómo lo apoyamos en relación con estas cuestiones y ya lo hemos dicho no e incluso en nuestra enmienda a la totalidad también viene reflejada y pero yo le quiero recordar al señor iturrate el

dirigiéndose a los diputados dijo si nosotros somos los representantes y el cauce de esta sociedad debemos ser también el ejemplo a la misma con nuestro mutuo olvido olvido incluso dijo fue más allá que otros muchos con olvido nosotros no queremos el olvido pero nosotros queremos la justicia en relación con lo que era esa ley de amnistía

que descienda la sociedad efectivamente que esa campaña de olvido vaya ensanchándose

oírnos con respeto y concluyó su intervención diciendo señores la amnistía es un camino de reconciliación pero es también un camino de credibilidad democrática eso lo dijo

sesión yo creo que son palabras sabias y buenas y de construcción y de construcción

y que nos sigue acercando a los españoles yo creo que está claro no es decir hay que recordarlo también

alguna las tenía pero bueno él también ha hecho el recuerdo en su intervención de algunas de las cuestiones reflejadas señor

claro que se habla igual no se dice la ley de amnistía pero al hablar de las cosas que ustedes hablan en la propuesta

porque desde luego ustedes denuncian al gobierno pero es que el gobierno

en lo que se basa para tomar sus decisiones en relación con estas cuestiones es en una ley en vigor y en las resoluciones judiciales fruto de esa ley y entonces el gobierno de españa

o el conjunto del gobierno pues lo que hace es aplicar esa legalidad

con la ley de amnistía y por eso no se puede denunciar a un gobierno por cumplir la ley y por cumplir las resoluciones judiciales no se puede denunciar a un gobierno están ustedes cometiendo una injusticia una vez más

y nosotros desde luego siempre vamos a estar a favor como le hemos dicho de las medidas de reparación para las víctimas eso a favor

y lo seguiremos practicando en cualquier caso luego ya llegaban las provocaciones luego ya después han llegado las provocaciones del señor arzuaga lógicamente para el señor arzuaga es fácil

grupo político un grupo parlamentario constitucional que se mueve en las leyes democráticas bueno

hablaba de poso ideológico franquista antes también habló de falangismo bueno

es lo habitual mire hablaba usted además en la descalificación de la ley de amnistía hablaba como preconstitucional o no

no mire vamos a ver fue fundamento de la constitución o sea nada más y nada menos fue el fundamento de la constitución la propia ley de amnistía usted también insultará a la ley de amnistía la descalificará lo que usted quiera pero

y usted dice algo que no habíamos dicho nosotros nosotros decíamos pasar página no no nosotros queremos la verdad

el reconocimiento la reparación pasar página no pero entender lo que hemos aprobado

aprobado los grupos parlamentarios en aquella legislatura histórica es la ley de amnistía y que está plenamente en vigor y que ningún grupo de esta cámara que tiene representación en las cortes ha instado a la derogación

es así y hablaba además de cazadores de nazis el señor

mire los verdaderos cazadores nazis en españa ha sido la guardia civil en su lucha contra los referentes políticos que usted maneja

los verdaderos cazadores de nazis y por supuesto y por cierto a ver si pide a sus amigos que colaboren con la justicia

de trescientos crímenes sin resolver por parte de sus amigos de eta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna maneiro jauna zurea da hitza

señor iturrate incluso señor lehendakari señor

señor pastor señora idoia mendia van a mantenerse ustedes en silencio van a

van a hablar de los crímenes cometidos por el franquismo de hace décadas y van a permitir que una persona que nunca ha condenado a eta haya definido a los grupos políticos del partido popular y de upyd como

afines a los criminales defensores de los criminales van a permitir señores que ustedes son demócratas y además ustedes han firmado una iniciativa con quien

nos ha vuelto a insultar y me parece lamentable que ustedes no hayan pedido la voz y la palabra para haber inmediatamente roto esta iniciativa o al menos haber dicho que inadmisible e inaceptable

nos haya definido como amigos de los criminales o como defensores de los criminales

defina así a los miembros del partido popular que durante décadas se enfrentaron a eta y algunos de sus concejales fueron asesinados por la banda terrorista

no les da vergüenza hablaba el señor iturrate de perversión moral esto sí qué es una verdadera perversión moral que haya un miembro de un grupo parlamentario que nunca ha condenado a eta que insulte a dos partidos políticos democráticos y los demás se mantengan en silencio ese sí que es el silencio que sobra de la sociedad vasca

en la sociedad vasca ustedes son representantes de los ciudadanos lo que deberían haber dicho es que eso es inaceptable y que no lo van a permitir y que incluso inmediatamente

con eh bildu yo he tratado de plantear argumentos políticos y jurídicos de peso y tanto el señor barrio como un servidor lo hemos hecho con el máximo respeto reconociendo indudablemente que hubo víctimas durante el franquismo

a cabo crímenes horrorosos y también hemos recordado la ley de amnistía le ley de amnistía no lo aprobó upyd la aprobaron ustedes

están de acuerdo ustedes con esa ley de amnistía que ustedes aprobaron señores socialistas porque el señor unzalu en principio ha dicho que no que en absoluto se ponía en duda la ley de amnistía pues bien

la posibilidad de derogar la ley de amnistía salvo que los medios de comunicación mientan así se quedó recogido con lo cual igual ustedes tienen que aclararse

pero si es que esto no es importante señor unzalu

esto que le digo no es importante lo importante es lo que le he dicho antes lo importante

el silencio eso es lo vergonzoso

insulte a amigos de los criminales a los miembros del partido popular

izatea en la iniciativa del partido popular que subo a defender hoy a esta tribuna pedimos

que las hemos solicitado de forma reiterada a lo largo de otras

por un lado pedimos la revisión del euskera de la valoración de la puntuación que se le otorga al euskera a la hora de asignar los perfiles lingüísticos de cada plaza y por otra parte pedimos también una revisión de la puntuación del euskera en relación

a otros méritos como son la formación y la experiencia y pedimos por otra parte también que se respete la bolsa

vista de sustituciones y que no haya desplazamientos

de no saber euskera sabemos que estas situaciones se están dando sabemos que incluso se ha constituido una plataforma con la que hemos estado reunidos y nos han traído esta reivindicación y este problema que entendemos que claramente

garantizar el principio en condiciones de igualdad en el acceso a la función pública el euskera por lo tanto el conocimiento del euskera

sino que se ha convertido claramente en un elemento determinante a la hora de acceder a un empleo

y esto se puede hacer claramente también extensible al conjunto de la administración pública este hecho esta situación que como digo se repite

y también hemos presentado esta iniciativa a propósito de que el gobierno este gobierno ha anunciado la convocatoria de una nueva ope

que posiblemente se materializará por el próximo gobierno pero decía que esta situación está generando un claro malestar en los aspirantes

que ven cómo sus posibilidades de alcanzar un puesto en un escenario además de cierta incertidumbre laboral aunque estamos también en una incipiente recuperación económica

que la oferta de empleos públicos tiene su atractivo por la seguridad que puede dar en la vida de una persona el poder sacar una plaza fija en la administración pública y por eso digo que genera malestar porque ven cómo sus posibilidades

se ven mermadas en relación a las posibilidades que tienen otros aspirantes que sí pueden acreditar un determinado nivel de euskera cuando vemos que el conocimiento

más que un doctorado o se valora incluso más que todo

científico o la labor científica que haya podido realizar cualquier profesional que se presente a una

pública de empleo por lo tanto entendemos que hay que garantizar y que existe la necesidad de garantizar lo que ahora no se garantiza y lo que desde hace tiempo no se garantiza en las ofertas públicas de empleo en la administración

el principio de igualdad en el acceso a la función pública y que claramente el conocimiento del euskera o la necesidad de acreditarlo en un determinado

de ser discriminatorio nosotros defendemos desde el partido popular eta hau beti horrela defendatu dugu oreka bat egon behar dela

ese equilibrio entre la valoración del euskera como mérito en relación con otros méritos como la experiencia

la formación y que también esa asignación y esa exigencia que hagamos del conocimiento del euskera se adecue

porque a nadie se le escapa que no es lo mismo un ambulatorio

en un pueblo de la gipuzkoa profunda como puede ser oiartzun la pasada legislatura en el año dos mil nueve concretamente el veinte de octubre del dos mil nueve se llegó o se alcanzó en esta cámara entra varios grupos

socialista de euskadi upyd y partido popular un acuerdo que nosotros consideramos en su momento muy importante y lo consideramos también ahora muy importante

al departamento de sanidad a realizar esa valoración adecuada del conocimiento del euskera como mérito en las futuras ope de forma que se buscara ese equilibrio

y también se instaba al gobierno vasco a adoptar cuantas medidas y actuaciones fuesen necesarias para que se garantizara el principio de igualdad

de acceso en condiciones de igualdad a la función pública esan behar dugu argi eta garbi euskarari eskaintza publiko desberdinetan

behar du y claramente esa valoración excesiva que ha hecho que el euskera

se ha convertido en un problema de forma muy clara para muchos aspirantes que como decía anteriormente

claramente sus posibilidades nosotros consideramos que es necesario y que hay que compatibilizar y hay que hacer compatible

de forma progresiva en la atención en euskera y no tengan ninguna duda sobre ello avanzar de forma progresiva en esa atención

en una comunidad autónoma con dos lenguas oficiales pero que a la vez eso hay que hacerlo compatible porque si no se vuelven claramente con atraer y retener los mejores profesionales y así poderse seguir ofreciendo ofertando una atención de calidad

llevamos a que los buenos profesionales al tener un obstáculo para poder quedarse en nuestra comunidad autónoma busquen opciones más atractivas y además puesto que son buenos profesiones y tienen una experiencia acreditada una formación pues indudablemente tienen opciones

buenos profesionales a trabajar a euskadi una comunidad nos suponemos una sociedad abierta una sociedad receptiva también saber atraer a los buenos profesionales a los buenos médicos a los buenos enfermeros

lugares pero claramente y según los datos que se proporcionaron a propósito de la valoración de la última oferta pública de empleo dos mil catorce dos mil quince

claramente de desventaja porque yo me pregunto y nos preguntamos si ese diecisiete coma veintisiete por ciento

de otras comunidades autónomas que es el dato que nos facilitó el director de recursos humanos en una de las últimas comparecencias qué posibilidades tienen reales reales

finalmente también si se presentan esas personas en condiciones de igualdad con otros aspirantes porque luego cuando hay oposiciones en otras comunidades autónomas

concurren a comunidades vecinas sin ningún tipo de problema también creemos que es necesario corregir las disfunciones que se producen en las políticas de euskaldunización o mejor dicho las disfunciones que han producido las políticas

en donde claramente han pisado el acelerador en la política lingüística y además para no tener los resultados esperados gastando una ingente cantidad de millónes de euros todos los años en el caso de

como digo para no obtener los resultados esperados por lo tanto ya simplemente también por esto ustedes tendrían que hacer una reflexión

políticas que a lo largo de estos años han puesto en marcha

los propios eventuales que trabajan en osakidetza pues tienen claramente una dificultad de poder al final alcanzar una

debido al número de plazas que salen perfiladas y que desde luego a nuestro entender no se adecúan para nada

luego la valoración que se le otorga en relación al euskera en relación a otros méritos un pe ele dos dieciocho puntos

se valora más como decía que un doctorado que todas las actividades científicas que pueda tener cualquier aspirante

como el euskera es determinante en esa puntuación y sobre todo teniendo en cuenta los resultados por ejemplo de la

que fueron reflejados aquí por el director de recursos humanos en donde se nos decía que el setenta por ciento de los aspirantes habían superado la prueba de examen es decir la prueba de oposición siete de cada diez personas veintiocho mil quinientos ochenta y nueve

es decir con ese porcentaje de aprobados en la fase de oposición siete de cada diez

que la fase de méritos va a tener un valor fundamental en las personas a la hora de alcanzar un puesto en

méritos excesiva en relación a otros méritos como la formación o la experiencia

y prácticamente en una situación de mucha igualdad en la prueba del examen cuando llega la fase de valoración de méritos

dieciocho puntos como pasa a todos alcanza posiciones de ventaja o buenas posiciones

listado definitivo ya cuando se computan la valoración de meritos pero claro luego eso les sirve a esas personas para elegir destinos y esas personas que se han validado del conocimiento de la acreditación de un nivel de euskera

eligen las capitales de provincia ambulatorios situados en vitoria en bilbao y en san sebastián en donde la demanda del euskera es menor y tenemos

la contradicción de que plazas perfiladas en lugares en los que sí pueda haber una demanda del uso del euskera como en

en beasain en municipios también

de álava esas plazas se quedan sin cubrir e incluso cuando hay que llamar

está de tal forma montado que lleva a que haya muchas

desde luego para el partido popular y viendo que hay un anuncio de una nueva oferta pública de empleo es hora de corregir esa injusticia esta injusticia que se ha mantenido a lo largo del tiempo por los sucesivos gobiernos y que ha hecho que

vean frustradas sus expectativas de alcanzar un empleo pero pocas opciones nos da el partido nacionalista vasco porque a pesar de la evidencia de los datos y de la realidad y de la falta de resultados de sus políticas lingüísticas no cambia ni un ápice sus posiciones de lo cual obviamente no nos alegramos

vemos que no hay un ápice de reflexión cualquier caso nos alegramos de la posición del partido socialista que nuevamente pues ha cambiado porque tampoco fue una posición que ha sido mantenida

los años y anuncio la transacción que hemos llegado con tanto con el partido socialista

la posibilidad de haber alcanzado este acuerdo instamos en el primer punto a modificar la normativa correspondiente a la asignación de los perfiles lingüísticos de cada puesto de trabajo de osakidetza

también en un segundo punto que se garantice el principio de acceso en condiciones de igualdad tanto en la provisión de

el sistema actual de perfiles lingüísticos a fin de que se pueda computar una capacitación en euskera

de acuerdo a las exigencias comunicativas de cada puesto de trabajo es decir que revisemos una vez por todas también esa exigencia tan cerrada

de margen proporciona de los perfiles actualmente vigentes

el grupo popular inicialmente nos proponía que instáramos al gobierno a modificar la normativa correspondiente a la asignación de perfiles lingüísticos de cada puesto así como la valoración otorgada al euskera como merito en las futuras ope de osakidetza

realidad sociolingüística existente en las distintas zonas de euskadi y por otro lado que

el principio de acceso en condiciones de igualdad en la provisión de puestos de trabajo y en las sustituciones en

los principios que se defienden en esa iniciativa y compartimos también los argumentos expuestos durante su intervención por la señora garrido estando

añadir alguna cosa más y por eso presentamos una enmienda de adición gran parte de la cual finalmente no ha sido recogida en la transaccional por lo que en fin

efectivamente no pueda ver ningún tipo de discriminación lingüística en euskadi discriminación

gran parte de los grupos de esta cámara especialmente el partido nacionalista vasco han negado que existan pero

reiteramos que sí que existen esta es del grupo popular una proposición no de ley digamos parcialmente preventiva y digo parcialmente preventiva porque todavía no se sabe cuál va a ser la baremación que va hacer osakidetza en la futura ope y por lo tanto no se sabe qué valoración va a dar al euskera en todo caso sí es cierto y lógico

es que el pp tenga razón y vayan a volver a dar al euskera unas puntuaciones excesivas así ha sido en el pasado y seguramente así sea en el futuro

como el resto de la administración o muchos de los puestos

ahí sí que coincidimos con ella en que esa asignación de perfiles es elevada y que en muchos casos es claramente desproporcionada especialmente en algunas zonas del país vasco lo que es cierto y llevamos denunciándolo desde que upyd está en este parlamento es la imposición lingüística del gobierno y de los partidos nacionalistas tanto en educación como en la administración general y también en la sanidad

ocasión también por el grupo popular y pactamos una transaccional en dos mil once que decía literalmente lo siguiente el parlamento vasco insta al departamento de sanidad y consumo a que en cumplimiento del acuerdo del veintiséis de octubre de dos mil nueve rectifique la decisión de no variar la puntuación del euskera en la próxima ope de osakidetza

y la del resto de méritos y se garantice el principio de acceso en condiciones de igualdad a la función pública eliminando las discriminaciones que se producen

lo establecido en el párrafo anterior con independencia de otras actuaciones que considere necesarias para evitar agravios en la fase de oposición derivados del modo

pues ya defendíamos entonces lo que seguimos defendiendo ahora y unos años después también con este gobierno fuimos muy críticos y llevamos al pleno

un plan que decíamos en aquel momento no pretende normalizar el uso del euskera en osakidetza sino que esta lengua sea la que poco a poco se convierta

en las relaciones personales de los trabajadores y con los pacientes y proveedores y ese camino no se hace por el convencimiento se decía decíamos no se hace por un camino natural al ser la lengua mayoritaria y general de los empleados del ente sino que se hace por imposición con medidas coercitivas que llevan acompañados incluso incentivos económicos

y se deja claro que el euskera debe ser la lengua principal de comunicación siempre que sea posible y se encarga a los directivos para que actúen como verdaderos comisarios lingüísticos a la hora de conseguir el mayor número posible de unidades euskaldunes el mayor número posible de publicaciones en euskera el mayor número posible

incluso se lleva este cúmulo de imposiciones a terceros a empresas privadas a los servicios concertados y a las asociaciones de enfermos donantes facultades de medicina y enfermería

por imponer el euskera al conjunto de la sociedad por parte de los partidos nacionalistas

por la fuerza la euskaldunización de la sanidad vasca en fin estas son las cosas que hemos venido diciendo durante estos años por lo tanto es razonable es lógico que estemos de acuerdo con la iniciativa planteada por el grupo popular y que

esa enmienda de adición en fin he firmado en conclusión una transaccional con el grupo popular y con el grupo socialista contra la imposición lingüística a pesar de que cuando ellos gobernaron no movieron un dedo ante esta situación y dejaron todo
básicamente como estaba nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

con el euskera queremos fomentar el uso del euskera

cuidando algo muy claro evitando cualquier discriminación de los ciudadanos esta es la base concreta de nuestra posición hoy aquí nos hubiese gustado que hubiesen pasado aquellos tiempos en los que

de especialización creo que eso tenía que haber pasado ya y simular incluso que el mérito de euskera hubiese sido más importante

para acceder o no a una plaza eso es lo que queremos garantizar hoy también y pasa por la cobertura de plazas suficientes y por acomodar la exigencia lingüística a la realidad de cada zona y al perfil de cada profesional y a esto voy a ir al tema de los perfiles no creo que sea un debate de méritos

cuando se hicieron por vez primera exámenes de temario donde los aspirantes se medían por su conocimiento por el conocimiento de la materia que era donde se producía el corte y a partir de ahí sumaban méritos para dominar el euskera proponemos ir más allá

se transformen en una herramienta útil para los ciudadanos no en una barrera para los profesionales porque los perfiles su diseño tenían una voluntad

que se presten más servicios en euskera atendiendo a los derechos que asisten a los ciudadanos los socialistas vascos creemos que los perfiles lingüísticos deben ser una herramienta que proteja derechos y concilien los lingüísticos con los sociales y que no estén dirigidos

porque los derechos lingüísticos no pueden concebirse como un absoluto en una sociedad plural y abierta con realidades

no podemos pretender alcanzar un bilingüismo equilibrado queremos descargar la política lingüística de esa carga obsesiva por conseguir una sociedad bilingüe y a corto plazo queremos desprender a la política lingüística de la obligatoriedad del bilingüismo porque querer conseguir un bilingüismo equilibrado llevaría a forzar a una buena parte de la sociedad monolingüe

por lo tanto qué derechos lingüísticos les asiste a las personas castellano hablantes tampoco entendemos

sociolingüísticas que un bilingüismo homogeneizador equilibrado las instituciones pueden brindar facilidades para que vivan en euskera quienes así lo deseen pero no es este un derecho básico y fundamental una opción estrictamente personal las instituciones públicas no deberían fomentar activamente dicha opción

consideramos necesario encarar determinadas disfunciones generadas por la política lingüística gestionada hasta hoy y una de esas disfunciones es la rigidez del sistema de perfiles es el gobierno el que debe seguir

y la repercusión que estos perfiles han tenido hasta el momento analizando los logros de la política actual y corrigiendo sus disfunciones y es el gobierno el que debe corregir esas posibles disfunciones y adaptarlo

cómo se acredita cada perfil en comunicación escrita y en comunicación oral porque hoy tenemos una reflexión ampliamente compartida también

aunque algunos lo llevábamos advirtiendo desde antes es que la exigencia de un perfil la exigencia de la excelencia en el dominio oral o escrito del euskera no ha supuesto un aumento proporcional del uso del euskera eso explica todas las últimas campañas impulsadas desde el ejecutivo

y eso está ya comprobado una cosa es tener el perfil y otra

en las dos lenguas una cosa es acreditar un título y otra cosa es hacer uso de ese

a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad hay que establecer un nuevo sistema de perfiles lingüísticos si se revisan

en la relación de los empleados con los ciudadanos y se identifica en cada puesto si esa comunicación es oral y o escrita en un nivel más o menos alto el resultado serán perfiles mixtos o asimétricos

en el servicio público de salud todos entendemos que un médico puede atender a un paciente en euskera que exige alto conocimiento de comunicación oral y puede redactar el informe en castellano que exige un menor conocimiento o redactarlo en euskera con la ayuda de un programa informático como cuenta el personal de justicia sin contacto directo con el público lo que no exige un perfil de conocimiento escrito pero un celador por ejemplo que también es una plaza a optar en una no parece que requiera un alto conocimiento escrito porque nada en sus funciones lo requiere y sí lo puede requerir en oral y será mayor o menor según la zona en que preste el servicio

puede atender a un ciudadano que se dirija en euskera con conocimiento oral

pero tal vez no necesite mayor conocimiento de la lengua escrita que la que corresponde a ese perfil dos otra cosa son las jefaturas entre los mandos y la administración de osakidetza y la ertzaintza puede implantarse un modelo de perfil dos

atendiendo al uso que tengan que hacer de la lengua escrita frente

y en nivel dos pe ele cuatro habría que reservar en exclusiva para puestos en los que se deben crear textos bastante complejos

pero para que los que tengan el perfil hagan el trabajo correspondiente porque lo habitual sigue siendo que trabajen en castellano y los materiales se los envíen a los traductores distintas realidades lingüísticas distintas necesidades

acreditando su conocimiento en materia sanitaria miles que han hecho un esfuerzo que les permite tener hasta algún dominio suficiente del euskera que permiten atender

que después de la última ope se han quejado activamente de qué es lo que sucede y esto quizá

que convoque el gobierno la valoración del conocimiento del euskera se adapte a la realidad socio lingüística

y también a las exigencias comunicativas de cada puesto en octubre de dos mil quince acordamos entre todos que había que revisar cosas que hemos hecho también en amplísimos consensos entre diferentes entre nacionalistas y no nacionalistas

compartimos todos que es el euskera entre distintas sensibilidades hicimos la ley de normalización del uso del euskera que ha hecho posible multiplicar por tres el número de vascos que conocen el idioma entre distintos hemos hecho posible que se normalizara

entre distintos hemos puesto instrumentos que cuando ha hecho falta faciliten ese derecho a los ciudadanos a relacionarse con su administración

que eso ha supuesto un gran esfuerzo de comprensión por parte de la comunidad euskaldun y un gran esfuerzo de generosidad por la comunidad vasca

si quiera una relación con el euskera por las razones que sean aprendamos de verdad de este esfuerzo común y que una convocatoria de empleo

no se convierta en problema eskerrik asko eskerrik asko

vuelva a cambiar de opinión otra vez eta egia da noraezaren itxura argi argia daukazue

inondik inora elebakarra no el monolingüismo al que usted

también el representante del partido socialista ha hecho referencia gure zuzenketan eskatzen izan dugu araubidea

de selección procedían de otras comunidades autónomas y el consejero darpón lo dijo eso es la medida

como empleadores públicos y que realmente saben

si efectivamente hacen buenos exámenes porque de lo que se trata es

como siempre se ha cogido a los mejores profesionales con altas notas en las fases de oposición y si además tienen experiencia y además saben euskera evidentemente son lo que son profesionales brillantes que es de lo que tiene que nutrirse la administración pública y también en particular egin beharrekoa da

ha habido un avance significativo básico y subrayable

la superación de un debate falso ya que ha ayudado a superar ese debate falso en el que algunos insisten e interesado de médico bueno o médico euskaldún ya nadie cuestiona que los derechos lingüísticos sean parte inherente de la calidad que tiene que ofrecer

es que lo que queremos son los mejores profesionales y la excesiva valoración del euskera que se ha convertido en un elemento determinante y claramente discriminatorio

se vayan a otras comunidades autónomas a otros lugares y que incluso

no vengan claro si el dato señora gorospe de los aprobados en la fase del examen de la oposición es el setenta por ciento siete de cada diez pues me va a decir usted si no va a ser decisiva la valoración de los meritos y no va a ser decisiva esa excesiva valoración del euskera que se le da en relación a otros méritos dígame usted

de aspirantes que se han presentado de fuera de otras comunidades preferentemente cercanas dígame usted cuál va a ser la foto

en la fase de oposición ha habido un setenta por ciento de aprobados por lo tanto todos sabemos dónde va a venir el corte y cuál va a ser la fase

no se trata de que el conocimiento del euskera sea mejor o peor no no se trata del conocimiento del euskera eta euskararen ezagutza

al final si no estamos dando las mismas oportunidades a las personas que aspiran a una plaza

pues el euskera se convierte claramente en un elemento discriminatorio y en un elemento que

se llega a la disfunción en el sistema que al final los que precisamente se valen del euskera para obtener una buena puntuación luego eligen destinos en los que

no es proporcionalmente tan alta como en otros lugares y por cierto

estamos hablando de garantizar oportunidades estamos hablando también de garantizar derechos y los derechos de los euskaldunes están garantizados porque cuando una persona va a una administración a un consultorio

cosa distinta es que pasemos el rodillo y que queramos que todos los que están en un consultorio en álava en muchos municipios donde la demanda del euskera es muy pequeña ojala sería más pero es la que es mire no es la que es

su política lingüística de imposición no ha dado los resultados esperados al final

que nos afecta a todos que todos conocemos profesionales de la sanidad pública

de su esfuerzo a aprender euskera que puede estar muy bien pero con el solo objetivo de acreditar un perfil determinado luego guardarlo en el cajón porque ese perfil determinado pe ele dos dieciocho puntos les va a posibilitar acceder a un puesto en osakidetza nada más

quieren dar una vuelta de tuerca más en esos circuitos que han querido

vasca para la comunicación oral porque saben que luego no se habla porque saben que luego hay dificultades en el uso del idioma a mí eso como euskaldun

con mucho esfuerzo con muchas horas de trabajo para luego meterlo en un cajón bueno ya tengo el pe ele dos es que no hace falta esta es la realidad porque luego no lo usan no lo usan porque la lengua de trabajo pues es más fácil quizás

en medicina si no están mucho ni traducidos al español señora gorospe es que no están muchos ni traducidos al español qué quiere que le diga

un gobierno y unos dirigentes políticos se empecinan en negar la realidad se dan de bruces con esa realidad y ahí están los resultados de la política lingüística que ustedes han practicado durante mucho tiempo y ahí están

tendrán que hacer es que las tendrán que hacer porque al final me va a decir usted

no utilización partidista hombre la utilización partidista es la que han hecho ustedes la utilización partidista la que están haciendo ustedes del conocimiento de una lengua para discriminar claramente

en nivel suficiente si no estamos hablando de que no se tenga que exigir el euskera

de una forma con sentido común de una forma proporcionada equilibrada en relación a otros méritos de forma que se no se produzcan nuevas disfunciones en el sistema y de forma
que los que tienen oportunidades de quedarse aquí amaitu garrido anderea que son los mejores

en su informe de conclusiones entre otras cosas sobre perfiles lingüísticos

eta ez dut nik esaten da la comisión de seguimiento

no me extraña la falta de respeto del partido socialista de euskadi y del pp al euskera

claro lo que me extraña es la actitud del pnv esaten zuen

delegada sindical que representa los intereses de ese diecisiete por ciento del que nos alegramos que venga pero parece usted la representante del diecisiete por ciento de los que concursan en los procesos de selección

esa es su máxima preocupación que los de fuera tengan opciones y sabe lo que pasa que es que la máxima preocupación de este gobierno

la máxima preocupación es garantizar lo que tiene que garantizar que el servicio que se ofrece es de calidad en todos los aspectos teniendo como tenemos a las mejores y a las mejores profesionales del sector y además

pueda ofrecerse con la máxima calidad posible y esa máxima calidad posible en euskadi requiere también que pueda ofrecerse y que deba

liburuak ez daudela gaztelaniaz pues tendremos que traer ingleses porque claro

pero también ustedes en madrid que les hacen acreditar que saben castellano les hacen acreditar a todos usted conoce a algún profesional que trabaje en la sanidad pública vasca que no sepa castellano

uno ustedes filtro a todos y a todas y si no no pasa ni uno

supongo que en los mismos que los que leen los que son brillantes

algunos veníamos ya proponiendo antes baina nire galdera da y dónde consta su propuesta porque ustedes venían proponiendo antes

a este parlamento una propuesta una propuesta tan sencilla como valiosa una propuesta de creación de un registro único actualizado de manera permanente de las violencias machistas de la multidimensionalidad de las violencias

para ello en primer lugar me gustaría hacer referencia y poner en valor

bajo el lema todas las violencias tendrán respuesta tuvo lugar convocado por el movimiento feminista de euskal herria quienes unidas al unísono

urgente de replantear en primer lugar lo que entendemos por violencia creando

de asesinatos o de golpes hablamos de un entramado de violencias en nuestra sociedad y que desde luego desde el feminismo tenemos la responsabilidad de visibilizar y de combatir

de las múltiples agresiones pueden ser agresiones a mujeres lesbianas

todo esto es violencia machista por supuesto hay momentos como decían las propias compañeras en las que la noche y las fiestas son un potencial espacio de violencia

por supuesto hay que hablar evidentemente y así lo hacían ellas de la interpelación a las instituciones de la interpelación en este caso a esta cámara y al gobierno vasco de la necesidad desde luego de dotar de coherencia a las políticas que se llevan a cabo para erradicar o para combatir mejor dicho las violencias machistas

que vayan en detrimento de las condiciones políticas sociales culturales y laborales de la sociedad y por supuesto evidentemente en mayor medida en las mujeres

incluso de cáritas para que luego no se nos tilde de radicales el informe de cáritas en el que habla de la crisis sistémica que padece la sociedad vasca

y las múltiples carencias que tienen porque este sistema de garantía de protección social no les da la cobertura suficiente para que puedan tener unas condiciones mínimas

a la necesidad de hablarlo desde un punto de vista de derechos humanos y de vulneración de derechos humanos porque cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos lo que queremos decir es que no son sujetas beneficiarias las mujeres es que son ciudadanas de pleno derecho y que por tanto

tenga una reparación y desde luego unas garantías de no repetición la aplicación podemos hablar de la denominada ley integral de violencia machista del estado español que como en reiteradas ocasiones hemos dicho en esta cámara

obsoleta una ley que se enmarca en el ámbito de las relaciones de pareja

en cuanto a las diversas y múltiples violencias que sufren las mujeres y los cuerpos que se

desde este enfoque de derechos humanos se tienen que garantizar y además la legislación internacional lo establece se tienen que garantizar una serie de derechos que tienen las mujeres y los cuerpos víctimas de vulneraciones de derechos humanos víctimas de estas violencias

de cómo está funcionando en este caso

cómo está funcionando la realidad en uno de los ámbitos en el ámbito en el que más se habla que es en el ámbito de la violencia física hablamos en primer lugar y esto además no es que lo digamos nosotras es que hace falta simplemente hablar con las personas que están a diario trabajando por defender los derechos de las mujeres trabajando por atender a las víctimas de violencia machista al fin y al cabo haciendo

es clara estamos hablando de que los juzgados no son especializados

en el que una trabajadora de lanbide nos ha dicho que

en violencia machista es un protocolo que está colgado en la intranet eso es a lo que ustedes llaman sensibilización y educación en materia de combatir las violencias y esta es una realidad señorías que se da en todos los ámbitos y todas las áreas de este gobierno hablamos

por la creciente e impulso o aumento de las denuncias cruzadas de los maltratadores que denuncian a las víctimas también hablamos de un vergonzoso y alarmante aumento de los sobreseimientos estamos hablando que en el último año ha habido un ciento cincuenta y ocho por ciento de sobreseimientos se ha archivado o se ha sobreseído el caso

donde se ha aumentado un cincuenta por ciento de los casos o en barakaldo donde la cifra a pesar de ser algo menor también tiene una tendencia

estamos hablando de que hoy en día los lugares como los juzgados son un lugar hostil para personas aquellas mujeres que víctimas de violencia machista que van a interponer una denuncia por otra parte también hay que decir y esto además la propia consejera de seguridad así lo ha reconocido que las

adecuados con las condiciones mínimas para que quienes decidan interponer una denuncia puedan hacerlo en condiciones mínimas porque están en un mismo lugar en el que va

hasta una mujer que ha padecido treinta años violencia machista y esto no puede seguir así hay múltiples irregularidades

y en este sentido hay que decir que las cifras siguen aumentando las cifras han aumentado exponencialmente pero conocemos cifras de unas violencias y en contadas ocasiones y en diferentes momentos porque

el partido nacionalista vasco además en su enmienda de totalidad hacía referencia al informe anual de emakunde claro

con un informe anual no tenemos un mapa no tenemos una radiografía para poder hacer un diagnóstico real

esta negativa a llevar a cabo la aceptación de esta propuesta que hoy trae eh bildu precisamente porque en un mapa en un mapeo

que aborde la multidimensionalidad de las violencias

este gobierno para erradicar las violencias machistas desde luego no se entiende que se lleven a cabo discursos

no haya una voluntad clara y política de llevar a cabo cuestiones tan mínimas como un registro que se actualice de manera constante en el que figuren las violencias que permita a las organizaciones al movimiento feminista

y con todas aquellas que sufren las múltiples violencias tener

hacer un diagnóstico real para exigir a las instituciones como lo siguen haciendo con un mapa real el cumplimiento y la garantía mínima de defensa de los derechos de las mujeres y de todas aquellas personas que transgreden lo que está establecido la norma establecida también lo mismo pasa

defensoría por ley tiene que traer a esta cámara un informe anual en materia de las denuncias que ha habido en esta cuestión hemos tenido una comisión una comparecencia en este caso a petición de este grupo parlamentario no ha habido nada más

también ha habido una comparecencia solicitada por este grupo parlamentario con lo cual no se da ni siquiera las explicaciones pertinentes a los grupos parlamentarios

desde luego hay múltiples carencias por no hablar de lanbide lanbide que solo acepta considerar a víctima de violencia machista a

que exige a las mujeres víctimas separarse legalmente o reclamar a través de los juzgados las pensiones de sus hijos de inmediato para poder acceder a una renta de garantía de ingresos

la vivienda de inmediato o que se haga en un plazo ridículamente corto

que tienen las víctimas de violencia machista no hay un ambiente especial para ello no hay un entorno en los servicios de lanbide que les permita

tratar el tema de una manera lógica están completamente victimizadas por todas partes están doblemente victimizadas hay otra cuestión gravísima que el sindicato erne de la ertzaintza denunció en este cámara y es

especializados en materia de violencia trabajan de lunes a viernes hasta no sé si dijo

y a partir de ahí si tú vas a interponer una denuncia tienes que estar con una persona que no está especializada en la materia y tienes que volver posteriormente a volver

son mujeres son personas que viven verdaderos dramas de vida y que se les está victimizando y que esto es responsabilidad de las instituciones de todas las instituciones estas agresiones que tienen que sufrir a las añadidas ya en sus vidas tuvimos este fin de semana la ocasión de conocer múltiples testimonios de víctimas de violencias machistas y de conocer no solo sus dramas de vida sino cómo

han hecho que su victimización que su precariedad y que su sensación de indefensión aumente y esto no lo podemos permitir y por ello es fundamental es claro y es evidente que hace falta en primer lugar contar con todos los datos

de todos los datos que tienen que estar de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en este caso de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de violencia machista que tienen que estar encima de la mesa para que verdaderamente podamos hablar de un diagnóstico real

y en consecuencia podamos realizar políticas que ahonden en combatir estas violencias porque de lo contrario señorías seguiremos una vez más esto parece el día de la marmota hablando de esta cuestión

siguen cientos de miles de mujeres fuera reivindicando que esto sea a día de hoy una prioridad política eskerrik asko urrea

la señora urrea nos propone que instemos al gobierno a la creación de un registro público de las violencias machistas que se producen en

y gipuzkoa con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las violencias que sufren las mujeres

que consideramos que la creación del registro de las violencias machistas para álava bizkaia y gipuzkoa impulsaría la colaboración entre las instituciones los expertos y la sociedad civil

de nuestra sociedad señala también que eso requiere definir aquello que denominamos violencia machista y eh bildu nos recuerda algunas de estas violencias el acoso laboral los abusos sexuales las agresiones sexuales la violencia que sufren las mujeres que ejercen la prostitución la mutilación genital de las

acertadamente creo que hay que precisar qué tipo de información debería recoger dicho registro nos parece que es al menos una idea que tiene que ser debatida teniendo en cuenta que sigue existiendo violencia machista y que por lo tanto no hemos solucionado ni de lejos este gravísimo problema

nos parece que al menos tienen que ser debatidas desde luego el tema que nos ocupa es un tema importante es necesario poner todo de nuestra parte para erradicar la lacra que supone la violencia machista valoramos la labor de emakunde y su empeño en esta tarea

incrementando los recursos y mejorando las técnicas que nos lleven a acabar con la violencia de género

plantear nuevas propuestas nuevas medidas y nuevas iniciativas ser cada día más contundentes e intransigentes con esta lacra no podemos bajar la guardia como decía antes las violencias machistas siguen existiendo

y por lo tanto es muy recomendable que todos nosotros pensemos todos los días del año qué más podemos hacer para acabar con esta lacra es necesario seguir mejorando la buena labor que hasta ahora realiza emakunde es necesario que de las palabras y las buenas intenciones se pase a los hechos

sino también por dotarlos de buenas partidas presupuestarias de analizar también qué es lo que se ha venido haciendo hasta ahora qué es lo que puede haber fallado y qué más podemos hacer para acabar con este gravísimo problema es cierto desde luego que no todo es dinero a la hora de erradicar la violencia machista por eso además de defender también nosotros la creación y el mantenimiento actualizado de un registro público

violencias machistas dentro de nuestra enmienda hemos integrado como parte esencial

instituciones implicadas la violencia de género no es un tema solo vasco y por lo tanto creemos que hay que darle un tratamiento más amplio más global y más exhaustivo

los acuerdos interinstitucionales y reforzar iniciativas

y bastante completa sobre diferentes tipos de violencia contra las mujeres pero es necesario que estos registros sobre formas específicas de violencia contra las mujeres

en el que se recojan todos los tipos de violencia contra

para poder tratar todos estos tipos de violencia como parte de un todo y poder buscar soluciones consideramos esencial conocer la violencia contra las mujeres para a partir de ahí implementar todas las medidas necesarias para que todas ellas puedan ser eliminadas concretamente la mutilación genital femenina es un tipo de violencia

y también en euskadi por motivo de la inmigración y el incremento de mujeres procedentes de países en los que se lleva a cabo esta práctica salvaje según

mutilación genital según datos del diagnóstico de emakunde sobre mutilación genital femenina de junio de dos mil catorce

en los que se practica esta salvaje práctica habitan en el país vasco representando el cinco coma cinco por ciento

que residen en españa esta y otras violencias

ejerce sobre aquellas mujeres que no ejercen libremente la prostitución deben ser tenidas y los datos deben ser recogidos de manera periódica y de manera también exhaustiva cada vez es más necesario el mantenimiento y la mejora en la coordinación con el resto de instituciones implicadas con el fin último de erradicar la violencia de género por esa razón hemos presentado nuestra

la iniciativa original existe a día de hoy violencia machista es

por tanto hay que hacer más y creo firmemente que todos queremos hacer más y que todos podemos hacer más nosotros hemos planteado una enmienda que propone instar a emakunde a crear y mantener actualizado un registro de acceso público en el que se recojan las diferentes violencias de género que tengan lugar

todos los tipos de violencia contra la mujer por razón de su género

la coordinación con los organismos estatales encargados de la recogida de datos sobre violencia de género entre ellos el instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades

a mejorar el sistema de recogida de datos sobre violencia de género mejorando a su vez la coordinación con las comunidades autónomas manteniendo lo más actualizado posible el registro de datos

de su género es decir por el simple hecho de ser mujer entre otros los abusos y agresiones de tipo sexual la violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución o la mutilación genital femenina esta es por lo tanto nuestra aportación al debate de hoy es un asunto importante

iniciativa que presente cualquier grupo de esta cámara en relación a esta cuestión para repensar qué es lo que hace este gobierno y si efectivamente puede hacerse más no dudo del compromiso de este gobierno en contra de la violencia machista seguro que entre todos los grupos podemos acertar en poner en marcha nuevas medidas que hagan posible luchar más y mejor contra esta lacra

del grupo que apoya al gobierno es insuficiente porque propone hacer lo que ya se está haciendo y proponer simplemente hacer lo que ya se está haciendo nos parece insuficiente porque sigue violencia machista y puesto que existe violencia machista esto quiere decir que podemos hacer mucho más para erradicarla cuanto antes nada más y muchas gracias

los socialistas queremos una sociedad de mujeres libres libres para tomar sus decisiones

ni les acose por tomar sus decisiones en libertad

pertenecemos a la primera generación que hemos podido elegir somos las herederas de quienes lucharon desde la reivindicación en la calle al trabajo en el hogar al que recluyó la dictadura pero que en todos los frentes nos permitieron entre otras cosas estar aquí

que tanto han costado ganar y que con tanta facilidad vemos que se pueden perder y es algo que hay que recordar todos los días no solo el día ocho de marzo

que la historia de la lucha por la igualdad de las mujeres es el mejor reflejo de la fragilidad de los derechos de la necesidad de cultivarlos de defenderlos

y se toman decisiones políticas que los blindan ha costado mucho abrir la ventana del acoso del acceso a la educación la ventana del acceso al trabajo la ventana

y después de tanta lucha y conquista hoy el recorte de los derechos vuelve a situar a la mujer

en la parte más débil las que más sufren la precariedad las que más riesgos

y también las que más padecen la violencia en todas sus formas hoy hay muchas mujeres en euskadi que tienen miedo de sus parejas y no saben a qué ventanilla decidir o acudir para sentirse protegidas porque hay muchas jóvenes en euskadi que no ven el riesgo

que les controlen sus comunicaciones su forma de vestir su aspecto físico sus amistades estamos ante una grave violación de derechos

y también a nuestra dignidad como sociedad y lo que hoy pretendemos defender aquí

queremos conseguir sobre todo eficacia en nuestras respuestas a esta realidad los socialistas creemos que las instituciones deben multiplicar esfuerzos

a la violencia que sufren las mujeres a cualquier tipo de violencia

dignidad seguridad intimidad y desde luego hasta peligrar su integridad física sexual o psicológica por eso en la eficacia de este esfuerzo se debe contar con medidas como la recuperación de la ventanilla única de atención a las víctimas en euskadi

especializado de atención a las víctimas de violencia machista en todas las comisarías durante las veinticuatro horas los siete días de la semana

que sea de prevención no solo de reacción que se ocupe de la atención necesaria y personalizada para que las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia

no tenga que vagar para encontrar amparo y protección mujeres agredidas que reciben un trato diferente dependiendo del departamento

peregrinaje de ventanilla en ventanilla eso se debe evitar

no nos cansaremos de pedir esa necesaria ventanilla única hace falta una coordinación entre todas las instituciones locales forales y autonómicas porque todos nosotros y nosotras

ampliamente sobre la necesidad de luchar de forma integral contra la violencia machista pero es verdad que tenemos diferentes formas y sobre las medidas a adoptar y la forma de hacerlo efectivamente consideramos la violencia contra las mujeres un problema de primer orden político y social entendemos y así lo décimos que la creación de un registro público de violencia machista cómo va a prevenir la violencia

desaparecer la violencia de nuestra sociedad antes de crear el registro público creemos y entendemos que se debe precisar

información que resulte útil que información del victimario que se recoja que datos sobre la víctima denuncias sentencias etcétera

solo el fin de dar a conocer a la ciudadanía la violencia que sufren las mujeres cómo se va a utilizar esa información de privacidad son demasiadas las preguntas que nos hacemos no lo vemos nada claro desde luego mi grupo prefiere proponer

poner en marcha y sobre todo en funcionamiento efectos que puedan trabajar sobre seguro que este gobierno ha retirado proponemos y pensamos que sería más acertado crear la ventanilla única de actuación integral y coordinada que emakunde registre la totalidad de los casos que se atienden diferenciando entre los acontecidos en el ámbito familiar de pareja

las sufridas por quienes ejercen la prostitución la violencia de la juventud la mutilación genital y cuantas agresiones se producen contra las mujeres de forma que este registro sirva de base para abordar cuantas nuevas políticas fueran necesarias para combatir la violencia machista

vemos con preocupación cómo la violencia contra las mujeres tanto

siguen la violencia machista no desaparecerá si no acabamos con las causas que lo producen pedimos reforzar las campañas de prevención y sensibilización que acaben con el sexismo y pedimos medidas más contundentes

y quiero pedir un mayor compromiso a este gobierno el gobierno que suprimió la dirección de la atención a las víctimas de violencia de género

durante la pasada legislatura y que suponía una respuesta

eficaz y especializada a las necesidades de las víctimas de violencia machista pedimos con urgencia recuperar esta iniciativa pedimos la implantación de las unidades de valoración integral de violencia machista pedimos realizar las reformas legales oportunas para garantizar

lo hemos planteado los socialistas vascos la retirada de la custodia de los hijos e hijas a los condenados por violencia machista y puestos a pedir pedimos un gobierno en españa que asuma como asunto de estado la violencia de género nos afecta también a las vascas y los vascos

se afronte de manera integral todo lo que incide en las agresiones y discriminación a las mujeres para los socialistas la violencia machista no nace de la agresión y de la amenaza directa

de la discriminación y tenemos que atacarla de raíz por eso defendemos una ley

por el mismo trabajo defendemos medidas de emergencia social en hogares con riesgo de exclusión cuando quienes tienen mayor riesgo de pobreza severa son las mujeres defendemos incrementar la presencia femenina allí donde se tomen decisiones

en españa y en euskadi se pongan las bases de un país de mujeres libres de verdad y de vuelta a nuestra competencia

siempre trabajamos en la desaparición de todos los actos de violencia basados en el género que tienen como resultado posible o real un daño físico sexual o psicológico incluidas las amenazas los acosos o la privacidad de la libertad ya sea que ocurra en la vida pública

la proposición no de ley que nos trae eh bildu la señora urrea nos parece que tiene poco recorrido

sobre por qué se permite y por qué pasa esto y por qué no se trabaja lo suficiente el parlamento no debe olvidar ni un día

pero buscamos algo más que registros y estudios los registros y estudios

no deben ser un mero recuento por eso defendemos las medidas concretas que recogemos en nuestra enmienda y que en el siguiente turno explicaré

eguerdi on denoi yo creía que la señora urrea nos venía a explicarnos un poco las bondades

ha dado su perspectiva totalmente parcial eso sí generalizada de lo que ocurre en euskadi en materia de violencia y de políticas de igualdad al igual que

sail ezberdinen artean podría pasarme toda la mañana explicando y enumerando todas las acciones y políticas que impulsadas y coordinadas por emakunde implementa este gobierno en materia de igualdad de modo interdepartamental y también colaborando a nivel interinstitucional

me gustaría hacer referencia a estas dos ya que la señora urrea comentaba que única y exclusivamente han venido a nuestra comisión para informarnos acerca de los datos recogidos tanto en begira como en la defensoría una única vez y ya sabe usted cuál es la razón

seguirá viniendo y esto nuevamente un hito de este gobierno implementado por primera vez durante este gobierno dos hitos más

de las más recientes un programa de formación dirigido a mejorar la capacitación de las y los profesionales del sistema de atención a víctimas de la violencia contra las mujeres

en el enfoque de empoderamiento como estrategia y como horizonte de la intervención con las mujeres que se acercan a los programas o servicios en euskadi sea cual sea el ámbito de intervención ya sea el sanitario el educativo

y porque quienes trabajan en el sistema consideraron durante el diagnóstico de necesidades formativas que se realizó para diseñar la formación

y la práctica del empoderamiento por tanto diagnósticos

de ahí surgen luego todas estas iniciativas y aún así todo este trabajo y este esfuerzo no es suficiente para erradicar definitivamente este mal de nuestra sociedad que es la violencia

dice bildu en la justificación de la proposición no de ley que ha presentado que es imprescindible conocer la dimensión de las violencias machistas

y propone elaborar como he dicho un registro público de las violencias machistas

más allá de las que existen en las relaciones de pareja recogiendo también el acoso laboral los abusos sexuales las agresiones sexuales

y no es cierto que emakunde ha comparecido infinidad de veces en nuestra comisión para hablarnos de todas estas cosas

todos estos datos no es cierto no es cierto que también ha comparecido la consejera

no es cierto que también ha comparecido el consejero toña incluso el consejero aburto

una y otra vez en esta comisión aportando datos esos datos que dicen usted que tendrían a raíz de implementar ese registro es que no hace falta implementar ese registro los datos ya existen y encima están diferenciadas la señora

de los datos pero encima de los datos diferenciados de las diferentes violencias

eso es cierto y esos informes los tiene emakunde y esos informes están colgados en la web de emakunde sí son públicos hablaba usted de transparencia es que no tiene más que acceder a la web de emakunde

es que si esos datos son públicos están en manos del gobierno están en manos de emakunde elaboran el diagnóstico pertinente

a qué viene ese registro podría usted explicarnos a qué viene ese registro me gustaría
profundizar más en este tema pero como veo que no tengo tiempo lo voy a dejar para el segundo turno eskerrik asko eskerrik asko

señora presidente habla señora urrea en su justificación

y encima que ese diagnóstico sea el punto de partida para poner en marcha acciones para la prevención y así profundizar en esta realidad

así formulado suena muy loable pero lo sería más

pero es que yo puedo entender que usted proponga iniciativas como la concreta que habla para mejorar o para

de cero es un poco iluso también por su parte pensar que uno cuando llega a una cámara empieza con ella

colaboración entre instituciones expertos sociedad civil con el fin de desarrollar mediadas

estoy de acuerdo en que la violencia contra las mujeres va más allá de la violencia en el ámbito de la pareja

en cuenta por parte de emakunde o incluso puedo estar de acuerdo en que se tenga más en cuenta si cabe pero lo que no termino de entender es qué propone exactamente

he conseguido aclararme porque en parte yo entiendo que ya se hace

si además es puede ser hasta

que quiere incorporar sobre la información que quiere incorporar sobre qué indicadores sobre la privacidad o no de la información que quiere usted

llegados al extremo me preocupa que la información sea tanta tan detallada tan concreta y toda la que pueda tener la administración

pueda manejar la administración que al final acabemos teniendo listados de personas entonces

no lo veo de hecho hay información que se nos ha

por eso no entiendo cuando habla de informes datos estadísticas

un centro de documentación luego habla también de coordinación y colaboración interinstitucional yo en comisión y en pleno he podido

pero nunca pondré en cuestión que ya existe colaboración interinstitucional

ya existen acuerdos interinstitucionales y encima cuando habla de registro y de información no solo eso sino que

hay novedades en los últimos tiempos sobre sistemas de información a parte del observatorio sobre la violencia machista contra las mujeres concretamente hablo de un

puesto en marcha en el seno de estos acuerdos interinstitucionales que tiene como objetivo y si esto no es lo que está pidiendo

que habla entre los objetivos de este grupo que ya existe del análisis y difusión de las características causas y consecuencias

también de la realización de diagnósticos que permitan identificar la situación de la violencia contra las mujeres en la comunidad autónoma la evaluación de la eficacia de los recursos y servicios de atención a las mujeres víctimas de la violencia que ahí es donde en ocasiones hemos dicho bueno pues después de esa evaluación

hemos hecho iniciativas pero no puede decir que esos datos esa estadística esa información no existe es más desde hace un año esa misma

se acuerda y se compromete a aprobar los indicadores de alcance mínimos informar a todas las personas implicadas en la recogida de datos

a organizar el trabajo del personal competente en la recogida de esa información a habilitar los sistemas informáticos para los tratamientos de datos a recoger esa información en emakunde eso lo he sacado yo de la página de la página web indagando es más

con todo el sistema de indicadores con una información a mi juicio bastante exhaustiva entonces qué más quiere

no le termino de entender me hubiera gustado que en su intervención nos hubiera aclarado

lo que propone no lo ha aclarado y en su intervención más que ceñirse a su iniciativa que ya ve que no solo a mí sino al resto de los

bastantes dudas pues yo creo que ha hecho más un balance de gestión abierto el zoom y ahí se ha dedicado a sacar aquí encima de la mesa pues no sé

en esta legislatura y ahí claro nos deja un poco vendidos porque hay temas concretos en los que nosotros hemos hecho propuestas o tendríamos cosas que decir pero eso no era el objeto de la iniciativa ha hablado

es que ha hecho aquí un inventario de asuntos cuando de lo que se trata es de que nos aclare a los grupos para ver qué hubiéramos podido votar de qué registro está hablando

casi la dificultad la veo más en convertir tanta información en conocimiento y gestionarla

que en falta de información a lo mejor puede hacer usted una iniciativa para ordenarla de una manera

operacionalizar de manejar pero de información entonces qué quiere en el registro qué información quiere que esté en el registro

lo que quería decirles el registro el registro que solicitamos básicamente es la articulación de las diferentes instituciones de los datos procedentes de las diferentes instituciones y departamentos en una única base de datos no estamos hablando ni de sacar a la luz datos personales de las víctimas ni de agresores

y en diversos ámbitos y de manera discontinua que se articulen en una misma base de datos y que se actualice semanalmente

no es que lo pide euskal herri bildu es que es una petición que viene por parte del movimiento feminista

de dar atención a las víctimas de violencias machistas claro yo les invito a que se enfanguen un poco a que dejen un poco la institución de lado y que salgan a la calle que salgan y pregunten a la gente nada más y nada menos que

que les interpelaba porque les decía que sacan adelante

que no se llevan a cabo porque en el papel podemos ver un contenido maravilloso pero que luego no se ejecuta y es que es la realidad pregúntenle ustedes

pregunten a todas las expertas y a todas las personas que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y desde luego por combatir

soy una simple correa de transmisión de la realidad que hay en la calle les invito a que salgan a la calle es más

con que vayan fuera del gobierno vasco muchísimos días a la semana verán cómo las organizaciones sociales delante del gobierno vasco muestran sus manifestaciones salgan

de que se expliquen porque eso es lo que le van a decir eso es lo que va a pasar claro yo entiendo que el papel en este caso del partido nacionalista vasco sea defender lo que ya existe

en todos los casos pero es que luego esto pasa como en todo defienden lo que ya existe y valoran lo que se hace cuando la calle cuando la realidad nos dice otra cosa nos dice que el aumento exponencial de víctimas de violencias machistas

sin parar con que una sola violencia exista ya es un fracaso de este gobierno pero es que las cifras son exponenciales por tanto es un doble fracaso de este gobierno la ertzaintza

dijo por favor os solicito que tengamos formación por parte de este gobierno

que se dedican se supone expertas a tratar estos casos

las trabajadoras de lanbide pregúntenle a las trabajadoras de lanbide

a la buena o mala voluntad de las trabajadoras de las funcionarias públicas atender debidamente los casos pero es que además ustedes se han quedado en que la violencia se limita solo a los malos tratos o al asesinato estamos hablando de que cuando hablamos de violencias también

y en esos índices de precariedad entren en la página web de emakunde en esa que tanto están ustedes defendiendo y verán datos que se refieren el más actualizado

actualizada y que está acorde con las necesidades con la coyuntura y con la situación real a mí no me lo parece desde luego

han tenido una perspectiva parcial en este parlamento

hemos traído trajimos una propuesta de crear una ponencia que estudiara específicamente esta situación que se pudiera sacar de ahí un estudio concreto una base diagnóstica de este parlamento para que sirviera

combatir y a generar políticas claras que vayan precisamente al quid de la cuestión a la erradicación de las violencias ustedes saben que dijeron señorías que no

y duraderos saben qué pasó que no que no hubo recursos estables y duraderos que hay esos recursos esos miserables recursos que tiene emakunde seis millónes de euros

el plan de coeducación fundamental la prevención es la clave

y saben qué han hecho para la prevención han sacado un plan que lo tienen guardado en un cajón que lo llevan a los centros escolares en el que durante diez horas

según ustedes se va a generar un cambio de valores en diez horas les hablan de las bondades de la igualdad y a partir de ahí eso el profesorado
lo tiene que llevar a cabo en sus aulas eso no es serio amaitzen joan urrea andrea dos mil euros

no es serio no hay voluntad política y este es el resumen de legislatura

política para este gobierno porque si lo sería no se limitaría a hablar de asesinato o víctimas se hablaría claramente de vulneraciones de derechos humanos y desde luego

la lucha contra la pobreza y la desigualdad porque eso señorías tiene rostro de mujer eskerrik asko urrea andrea mistoa

insistimos en que la intervención contra la violencia de género tiene que ser muy específica y con propuestas muy concretas señora urrea aunque usted nos ha estado explicando aquí anteriormente

no existe ninguna propuesta concreta todo es muy ambiguo no sabemos las limitaciones que se van a poner en este registro qué datos pueden tener

la privacidad de las personas maltratadas y su protección cómo se va valorar y preservar los derechos y libertades de las mujeres que sufren la violencia

todavía no tenemos la respuesta entendemos que la existencia de un archivo o un registro puede contener una gran información de la persona afectada por violencia machista pero también incluso hasta de su familia si vamos más allá y desde nuestro punto de vista pensamos que se debe garantizar la preocupación sobre la accesibilidad y la protección de los datos y cómo se garantiza el derecho a que nadie sepa cómo vives quién eres cómo estás qué padeces qué te ocurre y qué estás sufriendo

estamos y estaremos siempre contra la violencia machista que sufren las mujeres y muy importante impulsar un gran pacto institucional político y social que consiga erradicar la manifestación más extrema de la desigualdad necesitamos un pacto de estado contra la violencia machista porque afecta a todas las mujeres que existen

el acoso laboral los abusos sexuales las agresiones sexuales la mutilación genital femenina queremos una sociedad en las que las mujeres vivan libres sin violencia debemos trabajar en medidas concretas de protección integral cuya finalidad

sancionar y erradicar esta violencia y prestar así asistencia a las mujeres que lo padecen y lo sufren por todo lo anterior dicho

creemos que es importante la recuperación de una ventanilla única de atención a las víctimas en euskadi con una coordinación entre todas las instituciones en la necesidad de luchar contra la violencia machista

rápida eficaz y especializada que no existan es lo que pedimos que no existan carencias en la protección y la asistencia de todas las víctimas

en nuestra enmienda recogíamos e instábamos a que el gobierno a través de emakunde

interdepartamental e interinstitucional para crear una ventanilla única de atención a las mujeres agredidas o amenazadas por razón de género de forma que puedan acudir a cualquier instancia y reciban una atención integral y coordinada

esa ventanilla única de actuación integral y coordinada emakunde registre la totalidad de los casos que se atiendan diferenciando entre los acontecidos en el ámbito familiar de pareja laboral los sufridos por quienes ejercen la prostitución por la violencia o agresión de la juventud

se produzcan contra las mujeres de forma que este registro sirva de base para abordar cuantas nuevas políticas fueran necesarias en esta materia

de abordar la violencia de género como un pacto de estado porque efectivamente nosotros defendemos la ventanilla única una ventanilla única un órgano unificado que de una respuesta integral y eficiente

víctimas de la violencia de género así como a sus hijos la violencia que sufren las mujeres debe ser y convertirse en una prioridad real que esta ventanilla única sea el órgano encargado de supervisar recursos coordinar y ejecutar los programas dirigidos a prevenir sensibilizar y atender a los casos de violencia machista consideramos necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia

como una prioridad política porque desde luego el partido y el grupo socialista tiene un gran compromiso y sensibilización con el tema de las víctimas

lleva y ha llevado la marca socialista siempre hemos elevado al máximo nivel el tema de la violencia de género reforzar la protección de las mujeres

en nuestra comunidad y en el resto del país muchas gracias eskerrik asko fresno andrea euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

nos parece estupendo que hagan caso a las manifestaciones y a lo que nos viene a contar el sindicato erne ahora me gustaría saber

de hablar de informarse sobre cuál es el nivel de satisfacción cómo valoran las mujeres maltratadas

que yo sepa quejas existentes dónde están dónde están esas quejas las conoce

según quien diga que siempre hay preferencias hablando del registro público

que no lo compartimos primeramente pues porque se pretende con la creación de este registro

así lo decía al menos en su exposición de motivos como medida para la prevención de dichas violencias machistas y esto desde luego no es una medida preventiva para nada puede dar lugar a muchas respuestas sobre todo y de todo tipo pero de prevención no tiene nada también a nosotros nos crea numerosos interrogantes la creación de este registro la proposición no de ley no delimita el contenido de ese fichero al que va a tener acceso la ciudadanía no se concreta que información sobre los maltratadores constará en el registro y qué datos serán accesibles al público

firme nos parece un terreno un tanto peligroso

machistas para garantizar su seguridad y en ocasiones su vida pero este tipo de iniciativas

inseguridades que después debería de solucionar el sistema judicial porque para la prevención del maltrato es necesaria la creación de un registro de maltratadores accesible a toda la ciudadanía o esa prevención se debe ejercer mediante otros recursos menos intrusivos en los

creo que sería suficiente con esta sentencia del diez de julio del dos mil que dice que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes

si además es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia juicio de necesidad y finalmente si la misma es ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas

en conflicto juicio de proporcionalidad en sentido estricto

por ahora de lo que eh bildu plantea en su proposición no de ley

por lo que no apoyaremos su iniciativa y el señor maneiro decía que

un caso hablaba usted de lo que solicitaba

en la manifestación de gasteiz cuando comparecieron en el parlamento en la comisión les pregunté no una sino varias veces en representación quién venían si

que pertenezca también a la consultiva de emakunde fueron incapaces de responder a esa pregunta no no no decían venimos en nombre del movimiento feminista claro que es muy amplio en euskal herria amplísimo no pertenecían a ninguna asociación en concreto o no lo dijeron en aquel momento porque pregunté varias veces

en el que representantes de la consultiva del consejo de dirección de emakunde hablan no estoy mintiendo lo puede usted ver

de los interesante que estaba siendo para ellas aportar que efectivamente les gustaría tener más fuerza pero que estaban muy contentas de lo que habían conseguido que era muchísimo en los últimos años y de hecho la representante de la consultiva decía que la mayoría de la propuestas que se habían hecho en el consejo de dirección y se había aprobado

por tanto se le escucha al colectivo y mucho y mucho sí que me gustaría terminar porque claro habla claro es que siempre esto es habla de la ponencia también claro en la ponencia ustedes decían claro es que

aportando mucho muchísimo solo les interesa lo que bildu pueda aportar esto es así esto es así y por eso se quedaron solos en la ponencia y no quería sacar este tema pero es que lo voy a sacar tristemente la semana pasada hubo casos de agresión sexual en iruña hubo unas declaraciones del alcalde joseba asiron que decía

que expresaba la profunda repugnancia que nos producen este tipo de agresiones sexistas manifestaba una vez más

agresiones cesen de una vez y yo creo al señor asiron yo creo

poniendo todas las medidas que están en su poder para poder erradicar este tipo de violencias pero también creo al lehendakari y también creo a cualquier dirigente responsable político de las instituciones amaitu mesedez vascas cuando ocurre este tipo de cosas pero a bildu no le valen

lo que hace el resto está mal pero lo que hace bildu está bien ahí nunca hay planteamiento curiosa
curiosa la manera de bildu y luego sí me gustaría eskerrik asko agirrezabala andrea barkatu presidente porque me gustaría que usted señora urrea terminara ya de una vez con esa mentira de que emakunde tiene

en este gobierno son transversales y el resto de departamentos todos ellos tienen
financiación suficiente como para hacer frente a ellas no son seis millónes de euros es más muchísimo más eskerrik asko y cuál es el corte el que ponga bildu como siempre diez quince veinte treinta y cinco el

señora urrea para que usted consiga exasperar a la señora arrizabalaga

que creo que es templanza en persona mire dice

bien en la oposición yo creo que no se ha explicado usted bien

porque claro nos tenemos que ceñir a la literalidad de lo que propone y cuando viene a esta cámara a defender lo que plantea y es que no nos lo en su primera intervención desde luego me ha generado más dudas

y luego ya dice no es que ese registro sería una base de datos con información que ya existe ordenada

entonces yo sinceramente tengo la impresión de que usted quería una percha para hacer aquí

el resto de portavoces también pero que lo qué es la propuesta no la ha defendido

qué datos la privacidad no ahora resulta que no que esa información que ya existe que hay que ordenarla hacer una base de datos y actualizarla semanalmente ya digo que

y luego nos habla claro es que es que su planteamiento desde cada una de las intervenciones y encima esto se va acusando a medida que se acaba

no nos neutraliza ni nos invalida para tener nuestras propias posiciones y nuestras propias

erradicar la violencia contra las mujeres y nos dice que no escuchamos a las mujeres no tengo para olvidar dos horas de comparecencia con

que pidió comparecer para informar sobre los objetivos ejes y marcos ideológicos

en los que se enmarca la manifestación nacional convocada por el movimiento feminista de euskal herria

y donde pudiera haber porque todos estamos preocupados por este tema y pudiera tener consenso y de hecho los ha habido usted al final siempre acaba

para poner a todo el mundo ya a la defensiva conmigo es que en esa misma comparecencia decía usted

un sistema que sostiene y reproduce esa violencia de modo sistemático adaptándose a los tiempos de formas sutiles y directas y ese sistema tiene nombre y apellidos y es heteropatriarcal capitalista neoliberal

más de la mitad de la población de las mujeres y aquellos cuerpos que se atreven a trasgredir este sistema heteronormativo sufran de manera sistemática una vulneración de derechos humanos

por las personas que gobiernan en las instituciones un sistema que es avalado y que se gestiona con políticas que se hacen para que nuestras vidas y nuestros cuerpos sufran de modo sistemático vulneraciones flagrantes

que nos pone a todos que es imposible llegar a consensuar con usted es que no se da cuenta

premisas es muy difícil avanzar de manera constructiva en algo

de hecho alguna vez lo ha hecho pero no sé lo que le pasa en los últimos tiempos que se ha propuesto

entonces insisto y encima nos traen una propuesta que no está definida que no está aclarada

que le aprobemos esta iniciativa gracias eskerrik asko

euskarako hedabide ez publikoetan erabiltzen den publizitate instituzionalari buruz es cierto que la finalidad de la publicidad institucional

a los medios informativos su objeto es como indica la ley vasca que la regula garantizar el derecho de los ciudadanos a la información

y promover a través de ella su participación en la vida pública en consecuencia la asignación de recursos publicitarios

a cada uno de los medios aunque puedan tenerse en cuenta otros factores

de la mesa sin embargo no podemos dejar de lado el hecho de que estamos en una comunidad bilingüe y que los poderes públicos han asumido compromisos ineludibles con las dos lenguas cooficiales y más concretamente con el apoyo a la que tiene menos potencia

esta publicidad institucional en los medios de comunicación en euskera no llega al tres por ciento siempre sin que se tenga en cuenta la publicidad institucional en etb en eitb se puede afirmar sin duda que nos encontramos en unas cifras muy reducidas teniendo en cuenta

especificábamos en la justificación de esta proposición no de ley

del uso del euskera en su artículo veintisiete establece que se fomentará el uso prioritario del euskera en la publicidad

hedabideetan egin behar dela nuestra comunidad autónoma euskadi cuenta con más de sesenta medios de comunicación en euskera y entre los sesenta se entremezclan prensa escrita televisiones locales radios

que cubren todas las zonas de la comunidad autónoma diferentes estudios han constatado que la publicidad local es efectiva

bien a la comunidad que habla euskera y es buena plataforma para distribuir los mensajes públicos en euskera

interdepartamental de publicidad institucional del gobierno vasco que analizó en la sesión del dieciocho de mayo del dos mil quince un documento de recomendaciones y criterios con la finalidad de distribuir publicidad entre los medios de comunicación hubiese hecho mención a la publicidad en euskera pero tal como lo podemos comprobar no se avanzó nada de esto en el documento que desde el uno de enero del dos mil dieciséis establece los criterios

y compra de espacios en los medios de comunicación social denok izan dugu beste aldetik ekimeneko gogoeta euskal hedabideen sektoreaz

genukeela gogoeta hau la enmienda

eajri nola ez su compromiso supone un avance en una normalización que siempre debe llevar

de verdad de todos los grupos hoy en esta cámara es una enmienda asumible es una enmienda justa eskerrik asko eskerrik asko

señorías yo creo que la buena voluntad del señor azkue ha dado pie al discurso del apocalipsis del señor isasi que todo está mal de que no se hace nada de que es tierra quemada en relación contra las políticas del euskera no es decir y su buena voluntad efectivamente ha dado pie

yo no he visto muy clara la necesidad de esta iniciativa señor azkue su utilidad práctica

de priorizar de la que usted habla yo creo que estamos hablando de cosas que

con bastante pienso que con bastante normalidad que se hacen con bastante adecuación a las necesidades y sin ir más lejos

a lo que tuvimos la oportunidad de que nos presentaran el otro día la memoria elebide dos mil quince la memoria elebide dos mil quince elebide como todos ustedes saben es el servicio de la garantía de los derechos lingüísticos

setecientos ochenta y nueve muchas de ellas la mayoría quejas pero no hay quejas en relación con la falta de publicidad institucional

la sociedad vasca es decir cuando hay las quejas dirigidas a la administración general de la comunidad autónoma del país vasco

donde estarían integradas esas quejas porque la administración general de la comunidad autónoma es la que contrata con los medios de comunicación la publicidad institucional esas quejas no existen no aparecen hay quejas relacionadas con la atención oral por no atender en euskera especialmente por teléfono

con nuevas aplicaciones informáticas en algunas relaciones escritas cuando no se ha actuado en bilingüe en la relación con el ciudadano con la administración en algunas señales de tráfico paneles

el señor baztarrika dijo que ya se estaban corrigiendo con modelos lingüísticos por no poder hablar en euskera en el trabajo ninguna con el tema de la publicidad institucional

una cuestión de un problema que vemos que no existe nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad en relación con esta cuestión decimos que el parlamento vasco

a que aplique criterios de eficacia eficiencia proporcionalidad y realismo en la contratación de publicidad institucional en los medios de comunicación de euskadi bueno

dónde tiene que actuar el gobierno vasco eficacia

y que les comunique algo que les pueda interesar y además entenderla que sirve para informar no para financiar

que se pretende con la relación eso cuánto cuesta y cuál es el resultado

proporcionalidad pues sí señor equilibrio no desproporción en la asignación de recursos acomodarlo a las necesidades realismo habrá que aplicar los recursos a los medios

y la respuesta a la realidad sociolingüística y a la compresión de los usuarios de los medios de comunicación

y realismo es decir no dinero para financiar o para primar a determinados colectivos dinero para informar y para comunicar

ni falsos patrocinios ni campañas partidistas ni gastos inútiles o estériles en cualquier idioma lo que la publicidad institucional debe de buscar es que un número de gente el mayor posible se enteré de

y que se dirijan a determinado colectivo de interesados o a parte de la población o a toda la población es decir en términos comerciales las necesidades del mercado las necesidades del público al que se dirige por eso señor azkue le digo que nosotros no apoyaremos la enmienda de transacción y que
votaremos en cualquier caso a favor de nuestra enmienda muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

sí gracias presidenta el grupo socialista inicialmente nos proponía una cosa y finalmente nos propone otra cosa

inicialmente nos proponía algo que proponía también con su enmienda eh bildu pero finalmente ha decidido alejarse inteligentemente de eh bildu para acercarse aunque sea peligrosamente al grupo nacionalistas vascos en definitiva

que nosotros instemos al gobierno vasco a que fomente el uso prioritario del euskera en la publicidad institucional y que instemos al gobierno vasco a que garantice que el quince por ciento del importe anual de publicidad institucional

publicados en euskadi y en euskera exceptuando la publicidad que hace e i te be nosotros no pensábamos apoyar esta iniciativa y tampoco vamos a apoyar la transaccional vamos a votar en contra de esta última auzi hau ondo aztertzeko

debe servir para ser soporte de difusión de las políticas públicas para acercar a los ciudadanos a aquello que hacen los poderes públicos y para informarles de programas servicios o actuaciones que les pueden interesar o en lo que están concernidos está la publicidad institucional no está para otra cosa beste galdera bat egin beharko genioke gure buruari nola egin dezakegu publizitate

eraginkorragoa en nuestra opinión esta respuesta también es clara

a la mayoría de la sociedad a esa parte de la sociedad que se quiere informar que le pueda afectar podríamos añadir también que esta publicidad institucional debería ser imaginativa y creativa para obtener el mayor impacto posible pero en todo caso debe llegar a todas la sociedad de la manera más eficaz

posible es decir hay que buscar siempre que la publicidad institucional llegue al mayor número posible de ciudadanos o a esos ciudadanos a los que interese esa información

y con el mayor impacto e independientemente en una lengua o en otra la que corresponda en cada momento en función de lo que se quiera informar y a quién se quiera dirigir esta idea choca radicalmente con algo que la mayoría de los partidos políticos llevan a cabo cuando gobiernan insertan publicidad institucional en función de sus intereses políticos

amigos con la inserción de anuncios o como forma de subvencionarlos o comprarlos la mayoría de ustedes es más

por lo que entiendo que lo que estoy diciendo ustedes lo conocen perfectamente otra actuación que nosotros no compartimos es la que pretende a través de la publicidad institucional

para conceder dinero a medios de comunicación que pasan o pueden pasar por determinadas dificultades económicas la publicidad institucional tampoco está y desde luego tampoco compartimos que se utilice la publicidad institucional para llevar a cabo una determinada política lingüística publizitate instituzionala

de estas últimas ideas conceder dinero a determinados medios de comunicación para buscar cierto acercamiento político

impulsar una determinada política lingüística se añade además a todo esto altas dosis de acomplejamiento por parte de los señores socialistas creo que no entiende por qué existe la publicidad institucional o cuál es su objetivo

beneficiemos a determinados medios y llevemos a cabo una determinada política lingüística y esto es un fraude a la sociedad hasieran esaten nuen bezala

helaraztea la pnl del grupo socialista es propia más acomplejados del lugar pero sobre todo lo que yo les quiero decir es que la publicidad institucional para esto no está para lo que ustedes proponen por otro lado por qué el quince por ciento y no el veinte o el doce o el siete por ciento

o espectadores es ciertamente triste que venga de un buen político como el señor azkue

la mala política que no deberíamos llevar a cabo beraz ez dago arrazoirik proposamena babesteko

concreta predefinida del dinero de la publicidad a los medios euskaldunes sobre todo porque no tienen impacto significativo de la opinión pública o al margen del impacto que tengan

a no ser que estemos buscando subvencionarlos de forma encubierta o darles una doble línea financiera ya que en la actualidad todos los medios euskaldunes están subvencionados por el departamento

además hay toda una serie de ayudas para el mundo editorial euskaldun muy superiores y mucho más generosas que para el resto de medios de comunicación por lo tanto hacer una especie de discriminación positiva adicional y otorgarles por ley publicidad institucional

no deja de ser una doble financiación institucional que atenta contra toda la lógica del mercado y del interés público en el manejo de los caudales públicos la inserción de publicidad institucional tiene que basarse en las cifras de difusión de los medios independientemente de la lengua en la que se editen independientemente de ello ya que son los ciudadanos los que eligen qué medio leen escuchan u oyen

esas son las cifras que deben mover las inserciones publicitarias independientemente insisto de la lengua en el que se editen o emitan y por esto nuestra enmienda de totalidad proponemos instas al gobierno vasco a que la inserción de publicidad institucional

contemplando para ello los parámetros básicos de audiencia y reparto proporcional de la misma entre los distintos medios de comunicación que se difunden en euskadi independientemente

transaccional que no dice nada que no supiéramos y que tampoco dice nada especial y que no va a servir

para nada sí que propone que el gobierno aplique el principio de acción positiva e incremente progresivamente el porcentaje que reciben los medios no públicos

atendiendo a criterios de racionalidad no habla de eficiencia no habla de eficacia habla de racionalidad la racionalidad es la actitud

por los impulsos eso significa racionalidad teniendo esto en cuenta entiendo que votaran la enmienda de upyd gracias eskerrik asko

oso oso motzean egingo dut yo pensaba que había aclarado el tema de que

ayudar a la financiación porque entendemos que la publicidad institucional y lo he dicho en mi primera intervención

en este caso atiende a una realidad distinta que no existía hace diez años entendemos donde está la realidad es difícil normalmente el acertar por qué lo hacemos pero he dicho que voy a ser muy breve hoy me debe de tocar recibir por todas partes es una mañana digna

qué pena ser normal y poder decir tranquilamente aquí que nuestra sociedad

allí se habla en castellano con una tranquilidad de la leche y que se requieren cuestiones y

sino que ser normal en la aplicación de lo que requieren nuestros ciudadanos una política normal y real yo creo que eso es la base y lo que nos exigen los ciudadanos a nosotros y con una cosa termino de verdad los socialistas no necesitamos ni a freud ni a ningún otro psiquiatra de verdad

tenemos complejos nuestro único complejo es acertar y eso sí que es verdad acertar con las políticas que merecen

gracias presidenta sí señor azkue efectivamente con la enmienda de transacción

la iniciativa original y la enmienda de transacción es algo que ya se hace

las dos cuestiones que vienen en la enmienda de transacción se hacen políticas de apoyo a los medios de comunicación en euskera se hacen y establecer el reparto de la publicidad aplica el principio de acción positiva incremente progresivamente el porcentaje menos no públicos en

y como yo le he dicho es poco útil esta iniciativa es decir no hay quejas nadie se queja en relación con la publicidad institucional lo hemos visto lo

y usted pide piden algo que ya se hace o sea que en ese sentido permítame que le diga y le entiendo

lo que propicia este tipo de iniciativas es ese discurso apocalíptico ese discurso del desamparo inexistente

y además lo que le permite otra vez arremeter contra la administración del estado contra el delegado del gobierno

elebide que es como usted sabe el servicio de garantía de los derechos lingüísticos quejas sugerencias en relación con la

pues las quejas han bajado en dos mil quince

esa administración del estado ese delegado del gobierno que siempre está pensando en cómo bloquear los derechos lingüísticos de los

quejas normales que se arreglan es decir que no hay ninguna agresión especial en ese sentido señor isasi

euskera y en el euskera a usted le gusta el mal rollo

cada día hay mejor rollo con el euskera cada día lo conoce más gente progresivamente se utiliza más

la gente en la calle los jóvenes pero a usted señor isasi

sí decía el señor barrio que esta iniciativa es poco

que ciertamente es poco útil o si se refiere a la original yo creo que la original más que poco útil es que es una iniciativa mala que propone cosas indebidas y que incluso me da la sensación de que ni siquiera el señor azkue

y ha terminado firmando una cosa distinta con el partido nacionalista vasco

racionalidad en todo lo que tiene que ver con el euskera pero en general con la política vamos a ver la publicidad institucional no está ni para subvencionar a determinados medios porque se encuentren en una mala situación económica

tratar de establecer buenas relaciones con determinados medios y que puedan convertirse finalmente en medios afines y tampoco está para impulsar una determinada política lingüística el objetivo de la publicidad institucional no es nada de eso el objetivo de la publicidad institucional es trasladar a los ciudadanos determinada información que les afecta y que les interesa conocer no es otro el objetivo de la publicidad institucional por lo tanto no tiene ningún sentido a que se incremente

unos determinados porcentajes concretos no tiene nada que ver con eso por lo tanto la publicidad institucional se deberá realizar depende para qué

en euskera en otras ocasiones debe aparecer en los medios con mayor difusión en otros efectivamente también tiene que recogerse en medios locales medios locales en euskera etcétera así tiene que ser para que esa publicidad institucional llegue al mayor número de gente posible en algún caso en la mayoría y en otros casos concretos llegue a un determinado perfil de la ciudadanía que está interesada o a la que le interesa recibir esa información esto es lo que se tiene que tener en cuenta

en mi opinión no tiene ningún sentido y además también evidentemente se tendrá que tener en cuenta que en euskadi todos sabemos castellano y no todos saben euskera y por lo tanto evidentemente la mayor parte de la publicidad institucional que se haga en castellano pero esto es lógico lógico se mire por donde se mire y evidentemente siempre defendiendo eficacia eficiencia y racionalidad señor azkue es usted muy normal un buen tipo y un gran parlamentario pero ciertamente

y al señor isasi que se cuide gracias eskerrik asko maneiro jauna amaitzeko

haré una breve intervención para despedirme de todos ustedes y a ustedes y a todos los parlamentarios con los que he coincidido en esta cámara agradecerles

el respeto y el cariño que me ha mostrado siempre quiero aprovechar esta intervención para pedir disculpas a quienes haya podido ofender con mis intervenciones he defendido siempre mis posiciones con firmeza con pasión incluso muchas veces con dureza pero nunca

en todo caso puedo asegurarles que siempre he pretendido combinar la confrontación y el debate político

pido disculpas hace más de veinte años

como concejal o diputado foral vine cargado de fuerza de pasión

más viejo más cansado pero también con la satisfacción de haber conseguido alguno de los objetivos deseados ese mismo compromiso lo seguiré llevando siempre seguir ayudando en lo que pueda

que sea más tolerante más justa y más igualitaria en estos años que he compartido con ustedes y con otros parlamentarios han sido años

los momentos muy importantes pero también los momentos difíciles y duros uno de los momentos más duros de mi vida fue sin duda tener que asumir la portavocía cuando nos faltó fernando buesa y digo cubrir como portavoz del grupo socialista a fernando porque a fernando no lo sustituí fernando era insustituible quiero

recordar a todas las víctimas de la violencia terrorista que siempre estarán en mi memoria hoy dejo la actividad parlamentaria lo hago por motivos personales y familiares para dedicarle más tiempo a mi pequeña

por supuesto no voy a dejar la política pero no será en plena dedicación

para que consiga tener el respaldo de la ciudadanía y hacer y sacar adelante los proyectos

una sociedad mejor quiero agradecer a mi partido

concejal diputado foral o parlamentario en tantas ocasiones

haberme designado como miembro de su gobierno ha sido un gran honor

a las trabajadoras de la casa especialmente a los trabajadores del grupo socialista su apoyo en mis tareas parlamentarias su cariño y su respaldo a los medios de comunicación

algunos periodistas viejos en el lugar ya saben cómo soy gracias de una manera especial a los compañeros y compañeras que durante este tiempo

y me han ayudado siempre a todos ellos muchas gracias señorías
nada más les deseo de corazón lo mejor muchas gracias eskerik asko